barne hausnarketarako eta debaterako tresna bihurtu dira las diferentes evaluaciones desarrolladas en los últimos quince años han contribuido sobremanera a este desarrollo generalizado de la cultura de la evaluación mediantes estas evaluaciones todos los centros educativos han podido disponer de información

y han recibido en cada edición su correspondiente informe de centro que ha permitido junto con las evaluaciones internas la actualización permanente de los planes y acciones de mejora de los centros

seigarren mailan eta bigarren hezkuntzako laugarren mailan dichas pruebas de evaluación cuyo pilotaje hemos realizado durante la segunda quincena de mayo en treinta centros de sexto de primaria y sesenta centros de cuarto de secundaria permitirán diseñar pruebas de evaluación que nos ofrecerán información relativa a ese perfil de salida

he de decir que la aplicación del pilotaje se ha desarrollado según estaba previsto sin problemas o con pequeñas incidencias en sesenta y tres centros

ha habido problemas y no se ha podido aplicar salvo a una parte muy minoritaria del alumnado en este sentido quiero subrayar mi agradecimiento a la comunidad educativa al alumnado madres y padres profesorado y direcciones de los centros

pero juntamente con eso creo que es totalmente necesario denunciar las posibles

que se han dado en algunos de los centros en los que no ha sido posible trabajar con normalidad y que han alterado sustancialmente la convivencia pedimos corresponsabilidad a todos los agentes educativos la escuela sola no puede tal y como me comprometí en diciembre con diversos agentes educativos

elaboraremos nuestro propio sistema de evaluación que dé respuesta a nuestro modelo educativo

con el inicio del nuevo curso para determinar nuestro propio sistema de evaluación porque esa ha sido siempre nuestra forma de trabajar desde el diálogo eskerrik asko uriarte andrea

es que el gobierno y este consejero respetan el acuerdo del parlamento de veintiséis de enero por el cual los grupos crearon una ponencia de autogobierno

los acuerdos para actualizar nuestro autogobierno respetando el ordenamiento jurídico

esta es una cuestión que estaba ya recogido en el acuerdo de gobierno suscrito en noviembre

y como representante de este partido me remito a la posición que ustedes ya conocen porque está registrada aquí desde enero del año pasado

los socialistas entendemos el autogobierno como la herramienta más adecuada para organizar la convivencia en las sociedades plurales para asegurar el respeto a los

y gestionar los servicios públicos que garantizan los derechos sociales y creemos que los procedimientos

el consenso y la legalidad son tan importantes como los contenidos

reforzando nuestras instituciones en el marco de una españa plural

la del gobierno es la de respetar la voluntad de este parlamento de construir consensos para esa actualización del autogobierno respetando el ordenamiento jurídico

detrás de las pancartas ustedes mañana se van a poner detrás de la pancarta con upn con pp

con vox y la falange casta no caspa señor arriola

señora iriarte no sé dónde están las novedades de lo que haya podido decir pedro sánchez pedro sánchez no ha dicho nada que no dijera hace diez años

posición del gobierno como socialista y así lo tenemos escrito

no me plantea ningún problema vivimos en un mundo con ciento noventa y cuatro estados

la reivindicación como nación de una comunidad que se autodefine como tal por razones culturales históricas o lingüísticas no presupone el derecho político a constituirse en estado en cuanto al derecho a decidir los vascos ya lo ejercemos todos los días en el marco de nuestro autogobierno los vascos decidimos

fíjese si decidimos que teniendo fiscalidad propia y recaudando nosotros los impuestos

poder financiar las competencias propias que tenemos a nivel de la comunidad

que es lo que en última instancia esconden detrás del eufemismo derecho a decidir

blindamos los derechos sociales en la reforma del autogobierno eso es lo que me preocupa y como demócrata defenderé que la ciudadanía sea consultada sobre los acuerdos que alcancemos sus representantes siguiendo siempre las reglas de la legalidad

recordaré que cuando mejor nos ha ido es cuando más hemos sido capaces de pactar entre nosotros y también con el resto de españa

constituir esta comunidad autónoma desarrollar nuestro gobierno contar con una sanidad y una educación públicas desarrollar la renta de garantía de ingresos la ertzaintza la e i te be o la normalización del euskera

estando o no en los gobiernos siempre ha participado en esos consensos

no los usaba para eso ahora tiene la oportunidad nos encontraremos si lo que quieren es un autogobierno más útil y seguro para los ciudadanos

si lo que quieren es imitar a cataluña y conducir a euskadi hacia el precipicio para eso

la negativa a facilitarles transporte escolar para el próximo curso dos mil diecisiete dos mil dieciocho

había solicitado transporte escolar para veintisiete niños y niñas que diariamente tienen que recorrer andando más de dos kilómetros por trayecto para trasladarse

lejos de la parcela donde se construirá la infraestructura definitiva la delegación de educación no ha motivado la repuesta dada a los padres y madres de dicho centro por lo que le hacemos la siguiente pregunta cuál es la razón

de vitoria gasteiz que supone la aprobación de los cambios en el plan general de ordenación urbana aprobado en su momento han modificado sustancialmente el número en las dimensiones de las parcelas destinadas a equipamiento educativo una vez conocida la futura ubicación del centro

las familias residentes en las proximidades del mismo solicitaron plaza en el centro

de todos modos con el fin de facilitar a las familias que lo desearan el ingreso en el centro se contempló la posibilidad de que fueran baremadas con cinco puntos

diecisiete dos mil dieciocho siendo una opción en ningún caso obligación de las familias acogerse al nuevo centro o acudir a los centros de la zona que realmente les corresponde centros ubicados en su zona a menor distancia y con la existencia de plazas disponibles

laborales y escolares la transformación de las estructuras familiares o bien como en el caso de aldaialde donde niñas y niños

y donde niños y niñas pasarán la mitad de su vida escolar y donde no existe transporte público vemos necesario flexibilizar la normativa y buscar soluciones de hecho la propia normativa ya recoge casos de excepcionalidad

del país vasco para detectar este tipo de necesidades dificultades concretas que se salen de la normativa y buscar una solución que es nuestra responsabilidad

que se han estado tratando en otras instituciones esta semana como son los institutos de agurain o de laguardia como ya he dicho la misma normativa en su artículo seis punto dose dice de forma excepcional y sin que sea exigible el cumplimiento del requisito de distancia al que se refiere el apartado c del artículo cinco

en atención a razones de especial dificultad en desplazamiento derivada de la ubicación del centro y teniendo en cuanta la oferta educativa disponible de la zona previo informe de la comisión a la que se refiere el artículo doce del presente decreto la excepcionalidad deberá ser explicada y razonada con indicación de los concretos motivos en el que se

es decir está fuera de la normativa pero son niños y niñas de corta edad que tienen que recorrer cuatro veces al día un recorrido de más de dos kilómetros es decir más de ocho kilómetros y con el clima característico de gasteiz

su ubicación definitiva y estos niños y niñas dejen de estar desplazados de su zona de referencia

que pueda ser utilizada por estas familias y poderse desplazar hasta el centro no podemos permitir que la poca previsión de su departamento a la hora de diseñar necesidades escolares en barrio jóvenes convierta a castigo diario a las familias

asistencial una educación que trabaje sobre el beneficio del uso del transporte colectivo por ejemplo para nuestro entorno

fiscalidad que van a enseñar en los centros y que puede ir a este tipo de servicios esto también es calidad educativa y como dije evaluable
y nos vemos el domingo en la fiesta de la escuela pública vasca mila esker eskerrik asko

señora macazaga en relación a la previsión me remito a mi primera intervención repásela

financiado por el departamento competente en materia educativa en su capítulo dos artículo cinco tendrá derecho a transporte escolar el alumnado que cumpla entre otros el siguiente requisito fundamental en las enseñanzas de educación infantil y educación privada que el domicilio de empadronamiento se halle en el área de influencia del centro

de entre todos aquellos cuya respectivas áreas de influencia lo abarquen

que se trate del centro que le corresponda por razón del itinerario vinculado al centro en el que hubiera correspondido finalizar la enseñanza primaria y sea el más próximo a su domicilio de entre

la obligación de la administración educativa de proporcionar transporte escolar a un centro libremente elegido de hecho como administración estamos necesariamente sujetos

y es que un tratamiento diferente a estas familias en atención a una opción libremente asumida por ellas nos llevaría a una aplicación cuanto menos desigual del decreto de transporte

andrea egun on guztioi señor consejero durante estas últimas semanas se han estado celebrando una serie de jornadas relativas a la revisión de las dot jornadas de participación ciudadana una revisión

allá por el dos mil quince una revisión necesaria a todas luces atendiendo a los cambios económicos sociales y culturales que estamos viviendo una revisión que tiene como objeto de adaptación a las nuevas situaciones una revisión

cambios globales para hacer frente a los nuevos retos y darles una respuesta adecuada

un instrumento fundamental que nos va a permitir afrontar esos nuevos y conseguir una cohesión y un equilibrio territorial mucho mayor en nuestra comunidad autónoma como decía unas jornadas que han tenido como escenario las tres capitales vascas para abordar diferentes aspectos como pueden ser

natural como inversión de futuro un instrumento que desde luego

que lo conozcan nuestros ciudadanos y ciudadanas y que participen de esa revisión en esas tres jornadas se han presentado el avance

sobre aspectos temáticos más destacados del documento con el fin de

de nuevas ideas por parte de la ciudadanía paralelamente además y con el mismo fin se está celebrando también un proceso de participación en la página web de su departamento por tanto a la vista de la celebración de estas jornadas y de la situación de la revisión de las

gracias señora presidenta señor andueza efectivamente lo que pretendíamos con estas jornadas era incorporar nuevos puntos de vista al documento de avance de las dot más allá de las recogidas hasta este momento y el balance es francamente positivo le voy a dar algunos datos en las tres jornadas

que a su vez representaban a asociaciones de vecinos culturales de jóvenes de mayores de discapacitados empresariales colegios profesionales sindicatos feministas ecologistas universidades parlamento y juntas generales gobierno vasco diputaciones y ayuntamientos

su participación en estas jornadas han sido muchos los temas que se han puesto encima de la mesa y que sin duda servirán

algunas de las aportaciones expuestas sin ánimo de ser exhaustivo

y por tanto cambiante y unido a ello está la opinión de que no es bueno caer en una planificación

tiene que tratarse de un documento que permita a partir de un enfoque estratégico de país una gestión del territorio dinámica y capaz de adaptarse a los cambios la segunda consiste en poner la planificación territorial integral

en el centro del territorio además nuestra estrategia tiene que considerar en línea con lo reconocido en la nueva agenda urbana de hábitat el derecho de la ciudad con todas sus implicaciones

de unas ciudades justas seguras sanas y accesibles

en la apuesta por mejorar la ciudad construida antes que en crecer una regeneración integral

de la salud del envejecimiento activo de la eficiencia energética de la accesibilidad universal y

el cambio climático también ha ocupado una parte importante del debate las evidencias los impactos y las soluciones tienen que tener su reflejo territorial y asegurar así

no solo en la ciudad sino también en el medio rural y natural el principal objetivo de la planificación es reducir las incertidumbres del futuro

no solo con fines climáticos sino en términos de salud y de sostenibilidad ambiental social y económica han tenido también protagonismo las infraestructuras verdes tanto urbanas como rurales y sobre todo las entremezcladas la idea de lo rural lo verde invadiendo lo urbano y es que además de servir como disfrute de los ciudadanos estas infraestructuras

y también en la reducción del riesgo de inundaciones por último otra de las preocupaciones crecientes es la transición a un modelo basado en una economía circular para que se reduzca al mínimo la generación de residuos y en este sentido

en este aspecto me preguntaba sobre mi valoración sobre esas jornadas no puede ser más positiva muchas gracias eskerrik asko

gracias señora presidenta miembros del gobierno señorías buenos días a todos

el pleno aprobó mediante un acuerdo dotar de medios materiales y humanos al turno de oficio para asegurar la efectividad del derecho que tienen todos los ciudadanos a la asistencia jurídica gratuita la pregunta que hoy le traemos es muy sencillita

desde que comenzó su mandato hasta hoy qué se ha hecho para asegurar que ese servicio funcione efectiva y dignamente y a partir de ahora qué planes tiene

para que se consiga el acuerdo que se tomó en este pleno muchas gracias

jaun andreok egun on guztioi señor ruiz de arbulo me pregunta por un acuerdo de este parlamento que recibió el apoyo unánime de todos y acuerdo cuyo punto uno tiene dos contenidos

manifestando la adhesión al turno de oficio y al derecho a la asistencia jurídica gratuita y otro efectivo

no le quepa la menor duda de que tanto yo como consejera mi departamento y el resto del gobierno vasco nos identificamos plenamente con los dos contenidos del acuerdo y bueno en el documento euskadi dos mil veinte que es el programa de gobierno

hay un apartado que se denomina una justicia de calidad y una de sus iniciativas expresa textualmente garantizar el acceso a la justicia de toda la ciudadanía y cuando así se requiera asegurar el acceso a una justicia gratuita esta declaración señoría está basada

la igualdad ante la justicia porque la entendemos como un servicio público esencial para ello vamos a mejorar

en la prestación del servicio tanto en lo que se refiere a los demandantes como a los profesionales del turno de oficio

y mejora de las condiciones laborales y procedimentales sabe usted perfectamente que este gobierno destina más de catorce millónes y medio en el presupuesto de este ejercicio para financiar la justicia gratuita que representa un cuarenta y dos coma siete por ciento del presupuesto de la dirección de justicia esa cantidad asegura

los gastos de funcionamiento y la formación continua de los letrados y letradas eskerrik asko san josé

yo le he preguntado por las medidas que ha tomado hasta ahora me ha dicho cuál es el programa de gobierno

y me ha seguido hablando del programa de gobierno y que se va a garantizar y a llevar adelante el sistema tal y como viene funcionando pero las medidas concretas que yo le preguntaba no me las ha respondido espero que lo haga en el segundo turno

qué pasa con el decreto que el señor erkoreka aquí presente ya negoció con los colegios de abogados la pasada legislatura y que quedó a expensas de finalizar los trámites administrativos

los colegios de abogados no saben nada sobre ese decreto usted dice que ya está hecho y ya está negociado

pero no se pone en marcha tenemos vigente el del dos mil doce que fue un completo desastre a decir

profesionales del turno de oficio que son los afectados amén de los colegios de abogados señoría usted sabe cuánto cobra un procurador por un procedimiento ordinario completo asistencia a las vistas

de todos los actos procedimentales hasta el final de la sentencia menos de treinta euros a usted le parece eso digno a mí no

que vienen a ser más o menos el diez por ciento de lo que se cobra en el mercado

dignificar el sistema con esos precios a parte del decreto lo que tiene que hacer usted es actualizar los módulos contenidos en ese decreto para que las personas que trabajan vocacionalmente en ese servicio porque desde luego por dinero no lo hacen porque se paga muy mal

son varios miles los profesionales afectados por este tema pero es que son cientos de miles de ciudadanos los que se ven

afectados porque son los usuarios de ese sistema no estamos hablando de un problema de cuatro profesionales no señoría

funcionar no solamente correctamente sino que además tiene que estar bien remunerado usted tiene que aprobar ese decreto y usted tiene que aumentar los módulos

gracias a las negociaciones del cupo va haber mayores remanentes en el presupuesto para este año rapíñele un poquito señora consejera coja dinero amplíe esa partida que dice usted que es suficiente que el señor erkoreka decía que sobraba dinero

que era necesario cobrar más consiga dinero auméntela y abone mejor las indemnizaciones que los profesionales que llevan a cabo el servicio merecen y por favor

me alegra señor ruiz de arbulo que su preocupación por la justicia gratuita

un grave daño a nuestro sistema de turno de oficio y de justicia gratuita a través de una iniciativa de la dirección general de tributos

el turno de oficio como todos y todas sabemos por suerte ese escollo está superado puedo anunciarle también que en nuestro afán por mejorar

estamos tramitando ese decreto regulador del que usted

con los que mantenemos un contacto continuo y fluido y espero que en el momento de su publicación cuente con el apoyo de todos los sectores concernidos está en tramitación

y prevemos que su publicación sea a primeros del año dos mil dieciocho los objetivos que nos hemos señalado se basan en la necesidad de incorporar cambios legislativos operados en las recientes reformas estatales por otra parte queremos flexibilizar el sistema creando una comisión de asistencia

departamento de trabajo y justicia deseamos simplificar y minorar las cargas de gestión ciudadanos abogados y comisiones de asistencia jurídica gratuita y en fin nuestro decreto perseguimos la máxima agilidad y eficacia en la gestión continuaremos sufragando los gastos de iva del sistema y no le quepa la menor duda de que consignaremos las partidas presupuestarias adecuadas que lo aseguren en definitiva el objetivo

deje de tener acceso a la justicia por falta de recursos eskerrik asko

gracias señora presidenta buenos días señores consejeros señor consejero le pregunto en nombre del grupo popular por el dique de tres metros de alto por tres coma cinco kilómetros de largo que ura pretende ejecutar en el río zaia ahora le llaman proyecto de prevención de inundaciones

proyecto enmarcado en el arco de la innovación a día de hoy no está claro cuál es el verdadero objetivo y la dimensión real usted espero que nos lo diga lo que sí sabemos es que en estos diez años nadie de ura se ha preocupado de presentar el proyecto a los vecinos de los pueblos afectados de informarles gereña uribarri estarrona mendoza legarda mendojana artaza lopidana hueto arriba y hueto abajo tampoco a los usuarios propietarios de los terrenos afectados

cerca de trescientos hectáreas afectadas la falta de comunicación y transparencia ha sido total el tribunal superior de justicia del país vasco ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo presentado

contra el dique del río zaia y la pregunta es señor consejero si es criterio del gobierno crear una mesa de

para revisar el proyecto del dique y proponer uno nuevo que

garantizando de esta forma los intereses de las partes afectadas

gracias señora presidenta señora lópez de ocariz como es habitual la agencia vasca del agua no tiene problema alguno con las juntas administrativas que usted ha mencionado con el ayuntamiento de vitoria gasteiz

reuniones sobre variados temas incluido el proyecto que usted me menciona y por supuesto ura tampoco tiene ninguna objeción a que

sobre este proyecto sobre cualquier otro pero en cualquier caso señora lópez de ocariz

el proyecto y según plantea usted en su pregunta elaborar otro que subsane unas supuestas deficiencias habría que acreditar primero que tales deficiencias

señor consejero hablamos de un proyecto diseñado por sprilur y ura hace diez años que hoy carece de sentido lo llamaban proyecto enmarcado en el arco de la innovación hoy es difícil de explicar

miñano a cinco kilómetros jundiz con espacio suficiente para albergar industrias

nos dan un resultado de veintisiete hectáreas de polígono pero una ocupación y afección de doscientos cincuenta de suelo de alto valor agrícola esto es insostenible económicamente socialmente no supera el plan agroforestal por ejemplo no se ha realizado un informe de impacto ambiental ahora nos dicen que el polígono industrial no y le voy a decir el diputado general de álava lo decía en octubre en

yo no creo en ese proyecto que se desarrolló que se planteó hace años no creo en él me parece que álava que foronda necesita disponibilidad de suelo

no no sé qué le parece a usted que diputación foral de álava se desmarque le ha informado diputación foral de álava

porque lo que decía el diputado general de álava es que el proyecto del dique es solo para proteger el aeropuerto es urgente proteger foronda y la pregunta es si es para proteger foronda la solución es el dique

decía el señor diputado general aun así yo entiendo la preocupación de los vecinos claro que la entiendo y creo que no ha habido información suficiente claro que lo creo creo que el proceso por parte de ura debía haber contado más con las juntas administrativas claro que lo creo

quizás haya que haberles explicado más desde el principio en qué consistía el proyecto y cómo se quería desarrollar

siga operando en caso de emergencia hemos debido estar cuarenta años en precario señor consejero

la diputación foral de álava le ha comunicado que se desmarca del viap si tiene sentido el dique

si el interés exclusivo es proteger al aeropuerto por qué según el diputado general de álava es obligatorio el dique ustedes insisten en el dique señor consejero creo que este proyecto si no está diputación ha caído esa es la impresión

señora lópez de ocariz la verdad es que me asaltan cada vez más dudas en contra de qué están ustedes del dique del proyecto de zona industrial junto al aeropuerto de proteger el aeropuerto

porque su segunda intervención la verdad es que me ha confundido bastante

un riesgo de inundación la prioridad del gobierno es la protección de las personas de las actividades económicas vulnerables y de las infraestructuras en especial

foronda y el proyecto aprobado por la agencia vasca del agua tiene

y este gobierno considera adecuado su contenido en base al objetivo que persigue ninguno de los argumentos aportados hasta ahora por las juntas administrativas

a un análisis técnico mínimamente riguroso tampoco este proyecto ha sido cuestionado por la confederación hidrográfica del ebro la confederación planteaba unas dudas ura se ofreció a despejar esas dudas con la mayor celeridad

en zaragoza se ha enviado el diecisiete de mayo una documentación complementaria y

la confederación en su caso no tenemos constancia de ninguna respuesta que implique la no corrección o la existencia de deficiencias técnicas en el proyecto y esa es la razón

no obstante por hablar no se pierde nada por hablar no se pierde nada si hay voluntad de hablar no será ura ni el gobierno vasco

que el proyecto planteado está correctamente diseñado y es adecuado al fin que persigue

también gestiona todo el parque público de viviendas del gobierno vasco también su parque propio de viviendas el parque cedido por los

es una sociedad que tiene una capacidad de gestión importante que queremos potenciar de cara al futuro en la medida que queremos responder adecuadamente al derecho

que viene acompañado necesariamente un crecimiento de la oferta

en la medida que se ha ido incrementando el peso de las políticas de alquiler la sociedad

y sus recursos personales y materiales dicho con datos en dos mil doce alokabide gestionaba un total de once mil cincuenta y dos viviendas

ciento treinta de ayuntamientos y cinco mil ciento cincuenta y cinco de particulares captadas por el programa bizigune

esta cifra de personal se ha ido incrementando ligeramente en años sucesivos

está situada en setenta y nueve personas para un número de viviendas gestionadas que en este momento es de

ciento sesenta y seis es decir mil ciento quince más que hace cinco años

porque los destinatarios de las políticas de alquiler son personas concretas con necesidades y problemas muy concretos

a nivel interno se ha consolidado el equipo directivo y de mandos intermedios para hacerlo más operativo se ha estructurado el área de atención al cliente y se ha desarrollado un catálogo de servicios

muy necesario para prevenir problemas y actuar cuando se producen

y además entre otras medidas se están implantando avanzadas herramientas informáticas para mejorar la comunicación con los usuarios y la gestión de avisos de incidencias en las viviendas

a nuestras necesidades eskerrik asko arriola jauna

gracias señora presidenta o sea que era esto sorpresa

me esperaba que usted

a medida que usted desarrolle sus objetivos de incremento del parque bizigune gestionado para alokabide

una película de que dos personas estaban desarrollando unas labores determinadas con una cualificación se les ha reconocido una cualificación de director interno

la responsabilidad el mérito del trabajo que venían desarrollando con un determinado nivel

me deja usted un poco a cuadros yo me esperaba otra cosa ciertamente

compartiendo como creo que comparte los objetivos del departamento de incrementar la política de vivienda en alquiler me iba a dar un toque de atención que sin duda estamos trabajando en ello no tenga usted ninguna duda de ver las necesidades que tenemos en la sociedad para poder dimensionarla adecuadamente para hacer frente a bueno los retos

a propósito estamos en un proceso de captación de viviendas en bizigune y animo a la ciudadanía a que siga prestando sus viviendas al gobierno

gatazkari buruz lopez de ocariz andrea zurea da hitza sí gracias señora presidenta señor consejero le interpelo
en nombre del grupo popular referente a la situación de conflicto surgida entre itelazpi y la junta administrativa de ariñez sobre la regularización de su monte

el gobierno vasco ya hizo un amago en mil novecientos noventa y ocho de regularizar la situación y reconocía que la titularidad

aquí el gobierno vasco solicitaba a la junta cesión gratuita de la titularidad tanto del terreno como del camino de acceso a favor de la comunidad autónoma vasca a lo que el alcalde de la junta administrativa asesorado por la diputación le comunicó que no está obligada a hacer cesión gratuita de la parcela ni del camino

que cuando se transfiere el centro no se transfiere la titularidad del suelo en dos mil tres se aprueba la ley de telecomunicaciones

no revisten el carácter de servicio público salvo para defensa nacional y protección civil dos mil siete se aprueba la norma foral de montes de álava que establece los requisitos para ocupación de monte público previstos en los artículos veinticuatro y veintiséis en dos mil diez es cuando la nueva alcaldesa de aríñez solicita a la diputación

expediente que se inicia y al que itelazpi responde que no tiene nada que aportar que no tiene nada que regularizar

un bien de dominio público destinado al servicio público y carecía de canon a satisfacer a la junta la diputación foral del álava emite informe y dice que no consta autorización

deducirse que todas las instalaciones son para comunicaciones de servicio público le recuerda la ley de dos mil tres le recuerda también

y solicite la autorización de ocupación correspondiente cosa que no se hace

se tarda casi tres años en autorizar que la junta administrativa y la diputación entrasen en este recinto que el repetidor que se transfirió en mil novecientos ochenta y cinco no implica la transferencia a la titularidad del suelo

que se debe declarar todas las instalaciones posteriores a la transferencia

no se comunica y además como decía se tardan dos años siete meses y tres días manifestando que no hay utilidad económica para concesionar algo que luego quedó

con el informe de auditoría el gobierno vasco itelazpi está manteniendo una voluntad deliberadamente rebelde a regularizar esta situación señor consejero la actividad

hasta el día de hoy porque ustedes siguen por lo menos

sigue en los mismos argumentos que en el año dos mil once además el gobierno está demostrando una actitud contraria a la transferencia que tanto predica

espero que nos resuelva algunas de las cuestiones que aquí planteamos al señor baños y que desde luego no contestó

ha servido para la paralización del expediente administrativo por

íntegramente participada por el gobierno vasco no abona a los pueblos cantidad alguna por la ocupación

y las empresas vinculadas al ejecutivo vasco pagan su canon por estar allí

itelazpi pero no nos quedamos en usar un espacio que es no suyo y no abonar una renta canon

arrienda a terceros parte de lo ocupado señor erkoreka esto podía ser titulado de aquello de cómo rizar el rizo o cómo ser un okupa y además rentabilizarlo ayer por casualidad leía en el blog del presidente del araba buru batzar

uso ilegítimo de un bien público y decía más

oiga pues ustedes han perfeccionado esto porque cómo llamará el señor suso

público y además rentabilizarlo sin pagar nada cómo llamaría sería interesante que escriba en el blog algo sobre este asunto itelazpi

repartidas por la geografía vasca únicamente pagan canon tres de ellas mientras que las otras están funcionando sin revertir nada a los propietarios de los terrenos en la mayoría de los casos las juntas administrativas y ayuntamientos de pequeñas localidades

autorización de las diputaciones y licencia de actividad pero itelazpi

así el importe neto de la cifra de negocios de itelazpi es de doce coma seis millónes de euros por prestaciones y servicios esta cantidad nueve coma ocho millónes de euros son del sector público de e i te be de seguridad del gobierno vasco de la red de meteorología nosotros entendemos que itelazpi

debe sujetarse al menos a las mismas reglas que el resto de los operadores

itelazpi presta un servicio de interés general pero solo una parte del mismo tiene la consideración de servicio público porque el director baños de itelazpi nos insistía en el servicio público hay que decir que hay muchas administraciones que prestan servicio público

religiosamente por lo tanto no llegamos a entender la cerrazón de itelazpi de no

el canon que correspondería por el uso de un bien

ocupa terrenos públicos por los que no paga cantidad alguna mientras otros operadores sí lo hacen y luego están los que itelazpi acoge en su seno porque

cuando un operador va a instalarse y va a la junta administrativa a decir oiga cómo me puedo instalar le dice itelazpi

ven a mi seno que yo te acojo y qué es eso pues una competencia desleal porque sí que hay operadores que operan fuera que están ubicados fuera de la red del recinto de itelazpi y pagan a las juntas pero itelazpi no y señor consejero francamente esto es muy difícil de entender

de atenerse desde nuestro punto de vista a los principios de neutralidad trasparencia y no discriminación todos los

para prestar los servicios que materializa itelazpi que actúan en una posición de privilegio con una incidencia real y afectiva en el mercado introduciendo un elemento perturbador para la libre competencia es lo que creemos

lo contrario yo creo que el comportamiento y la actitud del gobierno en el caso de itelazpi es ampliamente mejorable tanto desde el aspecto político como desde el aspecto jurídico

de respeto entre administraciones porque ha habido momentos de falta de respeto ante la diputación foral y ante la junta administrativa y creemos que eso

y además como le digo usted que es el consejero de la transparencia de la buena relación de la gobernanza

evitarlo y luego en el aspecto jurídico porque no se pueden dilatar tiempos a propósito para luego utilizar el tiempo

todo a sabiendas además no es admisible presentar alegaciones cuando se le requiere por ejemplo a itelazpi el título de ocupación del terreno alegando aspectos de competencia que sabe que no son ciertos

asumir una responsabilidad señor consejero nosotros

si tiene usted voluntad y su gobierno de que esto se reconduzca de tener una buena relación con las juntas administrativas donde tienen ustedes ocupando el espacio

ha llovido un poquito señor consejero y estamos en lo mismo nada más que yo le veo a la posición del gobierno en este caso en una posición muy cerrada y no reconociendo desde nuestro punto de vista y mientras no se demuestre lo contrario que tienen una obligación porque ustedes ya

con lo cual ya tiene reconocido que hay que hacer una contraprestación y por qué a unos sí y a otros no
eso sería muy importante que nos lo aclare nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

la cuestión que usted plantea es susceptible de un doble enfoque un enfoque parcial o si prefiere territorial o un enfoque completo

micro es decir desde la perspectiva de los intereses y aspiraciones de una concreta junta administrativa en cuyo territorio se encuentra instalada una antena un centro de comunicaciones electrónicas de los

aproximadamente en el ámbito territorial de la comunidad autónoma o desde la perspectiva macro desde la perspectiva de una sociedad pública que tiene por objeto la explotación

del país vasco destinada primordialmente fundamentalmente no exclusivamente pero sí con carácter prevalente a la autoprestación de servicios de tal manera que provea al sector público de la comunidad autónoma

de las comunicaciones electrónicas necesarias para que esta pueda llevar a cabo

funciones de seguridad funciones de emergencia funciones de protección civil de meteorología etcétera etcétera funciones públicas que no creo yo que haya que

de la legislación de telecomunicaciones del estado adicionalmente

servicios de difusión de televisión para personas que residen en el ámbito rural y a las que la cobertura ordinaria por supuesto una cobertura gestionada en términos estrictamente economicistas y de gestión empresarial no les llegaría en ningún caso si no hay

y de manera residual por mandato legal porque así lo exige entre otros el artículo nueve apartado cuatro de la ley general de comunicaciones

equipamientos de operadores privados pero insisto su función principal la prevalente es la autoprestación de servicios para el propio sector público estas dos perspectivas son legítimas ambas nada hay escrito sobre la necesidad de afrontar los debates públicos de una u otra manera y por supuesto tan legítimo es plantear este debate desde la perspectiva micro

desde la perspectiva territorial y parcial o desde el punto de vista integral y ya veo que usted tiende a hacer un planteamiento centrado en la perspectiva micro su exposición de hoy ha sido clara pero ha tenido otras exposiciones aún más claras y el texto escrito

es inequívoco a este respecto pero supongo que comprenderá que como consejero del departamento que tiene adscrito la sociedad itelazpi

jurídica y políticamente obligado a hacer un planteamiento más amplio un planteamiento macro una perspectiva integral en esta materia y le puedo decir que la posición que a este respecto defiende el gobierno vasco y que el director general de itelazpi ha tenido ocasión de expresar en más una ocasión en esta misma cámara no es

ni caprichosa es exactamente la misma por eso no es novedosa que viene defendiendo en esta materia durante los últimos años y que defendió entre otros quien ocupó la dirección general de itelazpi entre los años dos mil nueve y dos mil doce un distinguido militante del partido popular de su partido sí

que ocupó escaño en esta misma cámara y que ha desempeñado otras muchas responsabilidades públicas no es una posición por tanto novedosa en la cámara es una posición exactamente la misma

y por cierto la misma posición que defienden todos los responsables públicos de todas las comunidades autónomas que tienen también encomendada la gestión de redes de comunicación como esta de redes públicas de comunicación electrónica como esta

que a lo mejor le puede servir para ilustrar lo que es una posición unánime de todos los gestores públicos en relación con esta cuestión no es novedosa e insisto no es caprichosa

de los gestores públicos del partido nacionalista vasco no la han defendido así gestores de itelazpi del partido nacionalista vasco y gestores de itelazpi del propio partido popular hablados en su caso por presidentes de itelazpi en aquel momento que era la viceconsejera por ejemplo del ramo de administración pública

unánimemente siempre claro usted plantea un debate

reconducir una interpelación a un debate fundamentalmente jurídico no es que yo tenga problemas para afrontar un debate jurídico sobre esta o cualquier otra materia aquí o fuera del parlamento con usted en relación con cualquier asunto que plantee como usted comprenderá no sé qué formación tiene usted por sus palabras no es precisamente jurista pero no tendría yo problema en plantear una cuestión jurídica

pero francamente creo que las cuestiones jurídicas y los conflictos cuando los hay

y que los parlamentos están para otra cosa para hacer planteamientos políticos y desde luego los conflictos jurídicos no se resuelven a través de las mayorías parlamentarias sino a través de los tribunales tampoco creo que tenga mucho sentido que planteemos un debate en relación con el relato histórico de lo que ha sucedido en relación con esta antena a la que se refiere usted de zaldiaran en los últimos años usted ha hecho aquí muchas

objetables ha hecho un relato histórico que no se ajusta del todo a la realidad selectivo

descalifica a quien considera que tiene que hacer yo no voy a entrar en ese tipo de consideraciones porque creo francamente que no tiene sentido que la

sí le voy a decir que la posición del gobierno vasco en itelazpi no ha cambiado en esta materia desde que por lo menos desde que estuvo en manos su gestión de un director general del partido popular

en todos los centros de comunicación electrónica de la comunidad autónoma de euskadi incluido por supuesto

a un servicio público bienes de titularidad de la administración general de la comunidad autónoma de euskadi gestionados por itelazpi que es una sociedad pública cien por ciento que está integrada en el sector público de la comunidad autónoma de euskadi y además

plena legitimidad como operador de telecomunicaciones en el marco

aprobado por cierto con unas cortes generales de mayoría absoluta del partido popular como decía gonzalo machín

decía así han interpretado pacíficamente la situación jurídica todas las administraciones públicas implicadas sin tuviera que abonar canon alguno desde que se ejecutó su construcción

no es ni novedosa porque es la de siempre ni es caprichosa porque es la que también ha defendido los gestores de itelazpi de su propio partido en esta materia usted pregunta está el gobierno

por una solución acordada por supuesto la respuesta tiene que ser afirmativa claro que está por una solución acordada ahora bien

seguramente no se le oculta que la ley no ve con buenos ojos la transacción en el ámbito de la administración pública

intereses públicos y derechos y deberes que son irrenunciables y están considerados así por la propia legislación por tanto

libérrimas en el ámbito de la administración pública por eso nosotros estamos por un acuerdo pero no por cualquier acuerdo por supuesto que no desde luego por un acuerdo que suponga negar a la red

de bien de dominio público y que imponga fórmulas para la gestión por ejemplo

esto lo vamos a defender en todas partes aquí en el parlamento y en los tribunales si es que hay que hacerlo es que no imagino a un gestor

es que imagínese usted lo que puede decir el tribunal de cuentas si ve que un gestor público ha renunciado

que la normativa patrimonial reconoce a los bienes de dominio público

tampoco estamos lógicamente dispuestos a alcanzar un acuerdo que suponga renunciar a una gestión integral y unitaria de un servicio público

por el mismo motivo porque no podría ser comprendido ni explicado ni ante la sociedad ni ante los tribunales de justicia ni tampoco al tribunal de cuentas

de lo que es una gestión integral que procura entre otras cosas la cohesión social eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

señor consejero lo macro y lo micro asparrena etura kontrasta son macro o micro

de qué estamos hablando señor consejero de qué estamos hablando me parece una falta de respeto una falta de respeto

su respuesta a la cuestión de la que estamos tratando usted sabe perfectamente cómo está siendo el tránsito y

toda la documentación que le está llegando a su departamento y me viene a hablar de lo macro claro

kontrasta es macro estos qué son altos rubios de ojos azules o qué pasa

usted sabe que el servicio público que presta itelazpi se lo he dicho no llega al diez por ciento de toda la

de qué estamos hablando itelazpi no hace la misma actividad que hacía en el año ochenta y cinco cuando se le transfirieron las competencias mire yo

primera conclusión itelazpi no dispone de título para ocupar el monte catalogado de utilidad pública no titularidad del concejo de ariñez eso se la ha dicho informes de la diputación no lo digo yo

es que cualquier administración por muy servicio público que sea si ocupa un espacio que no le corresponde paga una renta

eso ya se lo ha dicho hay que regularizar esta situación sí señor consejero hay que regularizarla usted debería ser el primer interesado como estaba interesado alguien en el año mil novecientos noventa y ocho y por qué pues porque

no por una ampliación física de la superficie del terreno ocupado sino por el incremento de las instalaciones contenidas en el interior del recinto que alberga o da nuevos servicios

de ahí la necesidad de regular esta situación señor consejero

pues claro que sí claro que tiene que abonar y luego la explicación porque se abona a etura a asparrena a kontrasta se abona dieciséis meses a ariñe y se

por un expediente que ustedes propician lo hacen a sabiendas dilatan el tiempo y luego cierran el expediente

señor consejero usted es el consejero de transparencia de la gobernanza señor consejero creo que esto

el señor baños director de itelazpi dijo en esta cámara en varias ocasiones que cualquier tipo de modificación en los cánones supondrían

entiendo que esto supondría una renuncia a esta competencia si desmantelamos la red renunciaría usted a la competencia vendrían otros a hacerla sí no habría problema

no estaría mal me gustaría saber qué opina usted de estas palabras del señor baños por qué se paga un canon en algunos sitios y en otros no

ustedes presentaron un convenio a la diputación para exonerarse del canon

le voy a trasladar algunas preguntas que el señor baños no me contestó en su comparecencia igual tal vez si lo hace por qué impidieron durante novecientos cincuenta y nueve días que la junta administrativa de ariñe y la diputación foral de álava acudieran al centro de zaldiaran a ver lo que había

del servicio público que usted dice les tendrán que informar están equivocadas

el ayuntamiento de vitoria también está muy equivocado estamos todos muy equivocados somos una panda de indocumentados todos y usted es el único que sabe yo le reconozco todas sus averías su práctica su experiencia no tengo ningún problema en reconocerles todo

por qué propusieron un convenio a diputación que eximia del pago por qué
van a recurrir la última orden foral de la diputación foral de álava eskerrik asko lópez de ocariz andrea denbora amaitu zaizu

he sido todo lo respetuoso que tiene que ser un consejero que da cuentas y razones en esta cámara

y respetuosamente como creo que he hecho utilizando razones y argumentos segundo usted insiste en dos cuestiones en el relato y en el título jurídico muy bien yo he dicho que no voy a entrar ni en el uno ni en el otro pero fíjate hay dos precisiones que le tengo que hacer necesariamente me dice que

y que eso lo dice la diputación foral de álava si el título jurídico que tiene itelazpi en relación con esa ocupación está transferido por la propia diputación foral de álava pero me está diciendo usted que la diputación foral de álava está informando contra sí misma y está diciendo que el decreto del dos mil cinco perdón del año mil novecientos ochenta y cinco era un decreto ilegal que la

transfirió bienes de los que no era titular y de los que no tenía título de ocupación me está usted diciendo que la diputación foral está informando contra sí misma desde el punto de vista jurídico

en cualquier caso digo es un tema jurídico que yo no creo necesario entrar ahora en él si está en los tribunales que sean los tribunales los que resuelvan esa cuestión no tenga miedo

por otra parte tampoco tenía ninguna intención en repasar su relato de hechos pero claro cuando usted manipula los hechos de una manera tan escandalosa fíjese efectivamente el año dos mil once no se hizo una inspección que estaba establecida pero fue entre otras cosas porque desde la propia diputación foral de álava cerrillo directora del partido popular decía estoy de acuerdo con usted

las futuras situaciones jurídicas que puedan derivarse de esta cuestión había un acuerdo entre ambas partes no se suspendió la inspección porque no compareciera itelazpi sino porque ambas partes consideraban que en ese momento no era pertinente y había muchos casos

cuando este cruce de cartas está en el expediente y usted puede comprobarlo exactamente igual que yo no haga una lectura selectiva de la información según le interese

en las juntas administrativas sé que están que tienen ustedes mucho interés en competir con otros en ser los que ocupen la primacía en ese asunto

desde por lo menos que uno de sus miembros fue director general de itelazpi y desde luego es el planteamiento que en todos aquellos ámbitos públicos que gestiona el partido popular está defendiendo en relación con redes públicas de comunicaciones electrónicas en todos entonces hable con las comunidades autónomas que gobiernen ustedes y tengan este tipo de redes

en cualquier caso sí que le voy a dar una serie de datos que creo que son importantes para comprender esta perspectiva macro por la que usted se interesaba tanto fíjese lo que es la perspectiva y por qué creemos imprescindible que aquí la gestión de este servicio público se haga desde una perspectiva integral macro completa no desde la perspectiva parcial y territorial

en el ámbito territorial de la comunidad autónoma cincuenta y ocho prestan servicio en álava ochenta y tres en bizkaia y setenta y cuatro en gipuzkoa bien el noventa y nueve por ciento de gasteiz

pero un operador privado uno solo tiene tres centros en todo álava que cubren el noventa por ciento

y para cubrir al cien por ciento de la población hace falta cincuenta y

cincuenta y cuatro más que eso en clave de servicio público lo aporta itelazpi si usted quiere desmantelarlo todo perfecto que la cobertura no llegue a todas partes

mire para dar cobertura a álava a la población fuera de gasteiz

al del conjunto de la comunidad autónoma siete veces mayor fíjese

en bizkaia trece mil en gipuzkoa nueve mil y en araba sin gasteiz

no me diga que no está en juego la cohesión social no me diga que no hay que hacer una inversión desde la perspectiva pública que asegure esto que usted quiere privatizar itelazpi plantéelo en la cámara se debatirá plantéelo pero creo que ni su grupo parlamentario lo va a apoyar
porque presta un servicio público que es irrenunciable eskerrik asko erkoreka jauna eskerrik asko

mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi yo venía aquí a hablar de la interpelación que

y no hablar de la reforma de la renta de garantía de ingresos que se ha presentado por parte de este gobierno

hemos hablado y tendremos oportunidad de hablar yo me voy a ceñir en principio a responderle a las dudas e inquietudes que su grupo planteaba

y luego sí que igual le trasladaré alguna serie de cuestiones que me ha planteado que creo que nada tienen que ver con el debate que nos ha traído hoy a esta cámara

vigente teniendo como soporte los criterios que aclaran el articulado de la normativa en vigor y que han sido publicados en la web de lanbide y en el portal de la normativa vasca legegunea así ante las diferentes casuísticas que se producen

en todas las oficinas y también son útiles para que toda la ciudadanía vasca conozca de una forma clara y transparente las resoluciones que se adoptan

y con las instrucciones correspondientes con el objetivo de facilitar a las personas tramitadoras la resolución de los mismos y también

la resolución adoptada sea igual en cualquiera de las oficinas de lanbide seguimos trabajando como ya les he comentado en sucesivas intervenciones sobre esta misma cuestión

reuniones técnicas y políticas relacionadas con este tema hemos estado hablando con el ararteko y con su equipo citas en las que se ha puesto en común la preocupación

entre otras cuestiones y esas recomendaciones eran positivas y por eso las asumimos

y el conocimiento de los criterios de tramitación de la renta de garantía son elementos claves en el ejercicio de la transparencia y servicio público que el departamento desarrolla

y han de ser conocidos por la ciudadanía ya que inciden directamente en la mejora de la gestión de dicha prestación en la definición de esas instrucciones de trabajo

clara y concisa a las preguntas más frecuentes que se generan en la tramitación de los expedientes

por cierto no hay una suspensión cautelar alguna para ese criterio

se solicita como medida cautelar es una solicitud que hace el ciudadano la suspensión de la ejecución de algunos apartados del documento lo referido a la obligación que se impone al arrendatario para inscribir el contrato de arrendamiento en el registro de contratos

estos son los únicos dos puntos de las setenta propuestas

existe una propuesta de medidas cautelares propuesta insisto exclusivamente para estos dos puntos y cuyo plazo para presentar una alegación a la misma concluye el cinco

y estamos posteriormente a la espera de que se nos dé una respuesta por parte de los entes

por ello al no haberse estimado hasta ahora esa demanda continúan vigentes los criterios publicados y seguimos resolviendo en base a ellos sorprende en todo caso que de un documento calificado por la persona demandante como muy perjudicial para los beneficiarios de la renta de garantía de ingresos

de dos de sus puntos examinada la reclamación en sus aspectos más relevantes se dice que la misma puede tener efectos a terceros estableciendo obligaciones

sirviendo como ejemplo de ello como ya le he mencionado la obligación que se impone al arrendatario beneficiario de la prestación para inscribir el contrato de arrendamiento en el registro correspondiente y esto es como consecuencia de la aplicación de la entrada en vigor de la ley de vivienda todo contrato de arrendamiento se tiene que registrar

el documento de criterios lo que intenta es aclarar que sí que existen otras normas que pueden establecer obligaciones para los ciudadanos y como es este caso más allá de su carácter de preceptor de rgi tiene que cumplir también con estas normas por tanto el hecho de ser perceptor de renta de garantía

y cabe advertir que las resoluciones administrativas concretas de la renta de garantía fundamentan su decisión únicamente en la normativa vigente y nunca en clave de criterios vigentes en la fecha de la misma como es fácilmente constatable la publicación de los criterios en la página web de lanbide

pública y de buen gobierno y en espera a la

vamos a seguir resolviendo los expedientes en base a los criterios publicados el pasado

insisto no existen medidas cautelares de suspensión hemos preparado las alegaciones a esa reclamación presentada dentro de los plazos previstos

de la respuesta a las alegaciones que hayamos presentado usted

a lo que era la propia denuncia ha hecho una serie de comentarios y ha hecho una serie de aseveraciones que creo que

y que en este momento creo que tienen que quedar al margen de la pregunta que me hace pero cuando usted me dice que si estimo oportuno necesario suficiente que son seiscientos cincuenta euros para que una persona tenga un vida digna yo lo que sí que creo en base a esos documentos

que se realizó de una forma técnica objetiva en base a la encuesta de pobreza en base a la encuesta de desigualdades se estima que esas cantidades son cantidades

para poder llevar a cabo para salvaguardar las condiciones o las necesidades básicas de una persona que además tenemos que

de la prestación de la renta de garantía más doscientos cincuenta euros como consecuencia de la prestación complementaria de vivienda por tanto estamos en un debate intenso en un debate

pero yo espero que las aportaciones que todos hagamos sirvan para mejorar y consolidar un modelo que todos
queremos defender y del que nos hemos dotado eskerrik asko

ni ere etorri naiz horri buruz hitz egitea a hablar de la situación que se abre

con la demanda y lo que está pasando con los criterios de lanbide

porque eso puede clarificar mucho por dónde van los tiros es que todo está relacionado

dentro de esos criterios está la base fundamental con la que se ha ido fundamentando todo lo que es el desarrollo de la rgi eso es así y es que usted también lo reconoce porque me va a decir usted por qué están estas dos discusiones desvinculadas cuando usted misma en la propuesta de reforma que nos hace con esas quince propuestas recoge algunos de los que antes eran criterios y ahora son propuestas de incorporación a la ley

mucho más desproporcionadas y que el celo que se tiene con las personas preceptoras de la rgi

al que se tiene con otras personas de esta sociedad y le voy a poner un ejemplo vinculado con el padrón usted nos ha mencionado en su comparecencia

que hay un fraude con el tema de los padrones y que para evitar ese fraude

que se presente el padrón y que además haya una serie de documentos acreditativos de que una persona tiene la residencia en ese domicilio

bueno pues es una cosa bien sabida que en los periodos de matriculación en

hay muchas personas que defraudan con el padrón hay personas que utilizan el padrón para que sus hijos e hijas puedan ir a unos centros concretos o no

no organizan todo un sistema pensando que los padres y madres que llevan a sus hijos a la escuela son defraudadores

que está recogido en estos criterios y son elementos y paradigmas que están en la base para saber hacia dónde vamos con esta reforma es muy diferente

un sistema es completamente diferente a una serie de criterios que tratan de excluir a las personas del sistema cuando realmente lo que tenemos ahora entre manos

que estando en una situación de pobreza real no tienen acceso a este sistema ese es el verdadero problema las situaciones de pobreza que estamos viviendo aquí

no se quieren ver se quiere hablar de pobreza en términos exactos pero aquí deberíamos empezar a hablar

no esa cara de muñequito con antifaz pongamos cara real

o es que nadie desde ese principio de realidad y ese conocimiento de la realidad que usted nos decía el otro día conoce a personas que están trabajando en precario

o es que nadie conoce a mujeres que se han tenido que separar de sus maridos y han estado trabajando en sus casas sin percibir un duro tienen que salir de esa situación hacerse cargo de una familia percibiendo la rgi nadie conoce este tipo de situaciones principio de realidad ustedes nos lo piden una y otra vez aplíquenlo

que los principios que son válidos para la utilización de otros sistemas la universalización la calidad de vida

todos esos principios sean también principios rectores de este sistema eso es lo que estamos pidiendo y eso está totalmente relacionado con lo que ha pasado con los criterios de lanbide que son moralizantes que son criminalizantes que ponen a las personas que no sirven para organizar un sistema sino que lo complican y está directamente relacionado con el camino en el que nos podamos encontrar unas y otras en la reforma que vayamos a realizar no son discusiones que estén

lo pongo encima de la mesa y lo pongo encima de la mesa hoy porque creo que tenemos un reto compartido

máxima a la que tenemos que responder conjuntamente nuestra mano está tendida

en el que nos va a encontrar en este tipo de discursos moralizantes criminalizantes en los que se trate a las personas con diferentes varas de medir con desproporcionalidades y así euskal herria bildu
no va a estar a su lado señora artolazabal eskerrik asko eskerrik asko kortajarena anderea artolazabal anderea zurea da hitza

a una denuncia que un ciudadano ha interpuesto en un juzgado de vitoria

de defender desde su punto de vista algo que desde lanbide desde este gobierno estamos haciendo mal y usted vuelve a hacer el discurso que me parece el que usted quiere hacer sobre la rgi al que creo que

cuando termine de responderle a lo que realmente me ha preguntado quiero hacerle alguna serie de puntualizaciones nosotros desde el gobierno

para mejorar la gestión y desde luego no vamos a renunciar a mejorar la gestión queremos que el modelo sea eficiente y eficaz y vamos a tener y vamos a poner en marcha medidas las que tengan que ver con la reforma de la ley y otra serie de medidas de gestión que ya hemos aplicado

el modelo y el sistema que nosotros nos hemos dotado porque creo que a veces con discursos por parte de unos y por parte de otros se está cuestionando lo que es

que tenemos criterios moralizantes que estamos criminalizando

que desde luego ni es la voluntad de esta consejera ni es la voluntad de este departamento ni es la voluntad de este gobierno y que nos achaque a nosotros cuando hemos estado como le dije y le recordé en la comisión trabajando activamente desde siempre para fortalecer y poner en marcha este modelo que es envidia en otras partes del estado y que es envidia en otras partes de europa

que estábamos trabajando en lo que eran los criterios interpretativos y las instrucciones porque sí que es verdad que no existían unos criterios

de alguna forma en una situación de indefensión a las personas que tenían que hacer

a las posibles o bien suspensiones o bien eliminaciones de su renta de garantía y por tanto sí que creíamos que

cuestión relativa a la transparencia teníamos que hacer algo y por eso publicamos los criterios los publicamos

en la definición de esas instrucciones se da respuesta clara y concisa

el departamento de empleo y políticas sociales sí que va a contestar a la demanda interpuesta por una persona contra los criterios de aplicación de la renta de garantía y además la demanda o la queja que esa persona ha presentado en los juzgados tiene que ver con la aplicación de la ley de vivienda que de lo que no nos podemos olvidar es que hay otra serie de normas que se van aprobando

aquí lo único que se dice es de las setenta propuestas que nosotros hemos hecho y que están publicadas y que son criterios que no son propuestas estos son criterios de tramitación de la renta de garantía

que ha puesto la demanda que no son legales y que se adopten medidas cautelares y el juzgado de momento no ha adoptado ninguna medida cautelar lo que ha dicho es que tenemos diez

esa serie de alegaciones y ya veremos si tiene razón o no y en caso de que la tuviera nosotros no tendríamos ningún problema en modificar o eliminar esos artículos pero de momento ni tenemos suspensión cautelar ni de momento estamos cometiendo ninguna ilegalidad estamos aplicando la

esos criterios en principio son legales y por tanto vamos a seguir aplicándolos no tratamos de excluir a nadie

solamente parece que son ustedes los que conocen a gente que lo está pasando mal

y sabemos exactamente cuáles son los problemas y necesidades y en función de toda esa

buenas porque mejoran el modelo porque a las personas las protegen más

en función de si eres o no adulto o menor son superiores a las cuantías que están percibiendo y por tanto dejen de acusarnos de que somos personas que damos moralina y que criminalizamos a las personas que no que lo que pretendemos es ayudar

el denominado documento de criterio justo antes de que tuviera lugar una interpelación aquí en el parlamento para preguntarles sobre ello pregunté como es costumbre hasta la saciedad

otras cosas distintas además de la normativa se iban a aplicar a diferencia de otros momentos usted esta vez sí que me respondió le voy a citar textual del diario de sesiones

por supuesto es que eso es obvio no hace falta ni preguntarlo en la moción del veintisiete de abril llegamos a un acuerdo firmado por los partidos que sustentan al gobierno y le recuerdo hablando también con usted

una de esas cuestiones que había desaparecido tanto en el documento de criterios de abril como en el reciente de mayo

el día trece de mayo se publica en prensa un artículo que señala que habiendo consultado al departamento se va a aplicar entre otras medidas no entrando a cuestionar el fondo de la medida si no la necesidad de que las personas conozcan sus obligaciones para poder cumplirlas cómo justifica usted que pese a lo expuesto su departamento afirme estar aplicando obligaciones no recogidas en la ley como por ejemplo la obligatoriedad de no salir de la comunidad autónoma más de quince días al año

establece que la renta de garantía de ingresos es una prestación periódica y el derecho subjetivo es de naturaleza económica se trata de una prestación dirigida a cubrir las necesidades básicas de las personas

y así la normativa establece que las personas perceptoras de la prestación deben tener residencia efectiva e ininterrumpida en cualquier municipio de la comunidad autónoma

por otra parte la normativa también establece que tanto la persona titular como los miembros de su unidad de convivencia que se encuentran en edad laboral deben estar disponibles para el empleo

que además tiene que ser ininterrumpida y que tenemos que estar disponibles para el empleo y ese marco normativo establece que las personas perceptoras de la prestación deben encontrarse en euskadi

y esto está recogido en la ley de garantía de ingresos y están obligados a comunicar cualquier

de esta manera una persona que se desplace fuera de la comunidad autónoma estaría incumpliendo la normativa actual sin embargo a mediados de dos mil catorce y tras varias solicitudes por parte de las entidades del tercer sector

lo que le permite la posibilidad de desplazarse fuera de la comunidad autónoma durante treinta días como máximo sin perder el derecho a la prestación económica durante ese periodo siempre y cuando lo comunique asimismo y para facilitar a las personas perceptoras de la modalidad de renta básica para permitirles ese periodo de desplazamiento a las que tienen una

se les permite mantener el derecho a la prestación durante quince días pero tienen que comunicarlo y para ello cuando las personas perceptoras comunican una salida lanbide procede a suspender su obligación de permanecer inscritos como demandantes de empleo suspendiendo la demanda

de la misma manera se evita que sea convocado algún proceso de inserción

lanbide no impide a una persona que se desplace fuera de la comunidad autónoma sino que aplica la normativa permitiendo que lo hagan durante un periodo determinado sin que el derecho al cobro de la prestación se vea afectado y para ello es necesario que la persona notifique ese desplazamiento

la prestación se le informa de estos términos eskerrik asko

diga usted lo que diga no tiene lógica que usted obligue al cumplimiento de obligaciones

que las desconocen pero sobre todo ni es justo ni es legal y aunque le he dicho que no iba a entrar en el contenido sino en cómo justificaba esto usted voy a entrar un poquito en el contenido el hecho de que usted entienda que estar permanentemente disponible para el empleo es no poder irse a burgos por ejemplo a buscar trabajo

pero sobre todo insisto es injusto y no está recogido en la normativa la residencia efectiva se interrumpe según una sentencia del tribunal supremo cuando pasan noventa días

no pueden cumplir con su obligación estas interpretaciones hiper restrictivas de la normativa hacen que como las medidas que propuso usted el miércoles muchas personas que ya están en una situación de vulnerabilidad que debemos atender y proteger se queden en la estacada

tendrían que tomar otro tipo de medidas usted tendrá que saber con qué

insisto el derecho a la garantía de ingresos que no es un favor es un derecho

que ya he dicho y ya le he dicho a usted en más espacios el derecho a la información es un pilar del estado de derecho

ustedes con sus prácticas abusivas con sus malas prácticas están vulnerando el derecho de la población a ser informada y están jugando con sus propuestas a perseguir

y no me diga que estoy atacando al modelo de renta de garantía de ingresos porque yo ya lo defendía antes de estar aquí

que no saben que tienen estas obligaciones que cumplir diga usted lo que diga mila esker eskerrik asko guanche andrea erantzuteko artolazabal andrea zurea da hitza

hombre a mí me sorprende que me diga usted que no tiene lógica el cumplimiento de las obligaciones pues hombre que les tengo que dejar o que las personas pueden hacer lo que quieran pues no no es así yo creo que señora guanche

desde luego las personas son conocedoras porque se les informa en las oficinas de lanbide de cuáles son sus derechos

todas las cosas el resto del mundo vamos en dirección contraria este criterio de necesidad

y la jurisprudencia que usted dice dice el tribunal supremo

un traslado de residencia y si una persona quiere ir a burgos a buscar trabajo lo que tiene que hacer y así lo hacen

que no tiene ningún problema llama a lanbide habla con lanbide y le dice a lanbide oye ante esta situación qué es lo que tengo que hacer eso es verdad señora guanche

lanean aritu gara eta lanean jarraitzen dugu hezkuntza konponbiderik egokiena aurkitzen laguntzeko hemos mantenido y estamos manteniendo contactos y reuniones con todos los agentes implicados adicionalmente tal y como trasladé en mi comparecencia del pasado trece de marzo ante la comisión de educación

garantizando una matriculación en tiempo y modo que permita programar los ajustes necesarios para conseguir una respuesta educativa adecuada a la cual nos hemos comprometido y seguimos comprometiéndonos como apuesta de gobierno

en el municipio de barakaldo quedan plazas de sobra para matricular a todos los alumnos que todavía no habían ejecutado ninguna elección

hezkuntza proiektu bat garatzeko las desigualdades requieren una respuesta desigual para garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas

eragile guztiekin egon gara bai mi respuesta a su pregunta señora ubera tal y como le he indicado en mi anterior intervención hace escasamente un mes ha sido aprobada la proposición no de ley

de ninguna alternativa de cara a la asunción del proyecto educativo del centro esto es no se ha acreditado que el centro vaya a continuar con la titularidad alguna

señora ubera usted quiere un titular que culpabilice al gobierno cuando este departamento se ha ocupado de dar soluciones y de dar cumplimiento a lo acordado en este mismo parlamento eskerrik asko

la obesidad y el sobrepeso constituyen un problema de salud pública

y se puede decir que es más que un problema sanitario es un problema social relacionado con el nivel cultural con los recursos económicos con las condiciones de vida con el entorno familiar con el medio en el que se vive por lo tanto hay que abordar este problema desde una perspectiva integral es por tanto un problema transversal

ámbitos educativos sociales sanitarios la obesidad infantil está vinculada a una mayor mortalidad

en las personas adultas y condiciona claramente la aparición de enfermedades graves

casos de diabetes hipertensión arterial enfermedades cardiovasculares

de cánceres también no hay que olvidar las cargas que reporta al sistema sanitario social y la economía en general estamos hablando de un impacto de

anuales se considera que la prevención es el arma más eficaz esan dezakegu prebentzioa baliabide hoberena dela

obesidad es un problema de salud pública su asociación está claramente vinculada a otras enfermedades tanto en la niñez como la edad adulta así

necesario que se tenga que intervenir urge detectar el problema en edades precoces en edades tempranas mejor dicho y resolverlo por lo tanto en etapas precoces

hábitos de vida tanto en la alimentación como en la práctica del ejercicio físico komenigarria da horrexegatik

hay numerosos estudios que doy por hecho que el departamento y el propio

el último de ellos es el estudio aladino dos mil quince el estudio anterior

yo creo que nos podemos felicitar porque la comunidad autónoma del país vasca ha participado con un gran número de centros escolares comparativamente a la participación además de otras comunidades autónomas españa a través de la agencia española de consumo seguridad alimentaria y nutrición

naos participa en la iniciativa cosi en sintonía con la línea de colaboración con la oms

en la realización del estudio que anteriormente señalaba el estudio de vigilancia del crecimiento alimentación actividad física desarrollo infantil y obesidad el estudio aladino

estudio del año dos mil quince se observa la tendencia de la prevalencia de la obesidad se ha

en el sobrepeso se ha pasado concretamente de un veintiséis coma dos por ciento a veintitrés coma dos por ciento y en la obesidad

más baja no es las que más baja tiene porque

creemos que hay que seguir impulsando medidas que puedan ayudar a paliar la obesidad infantil y sobre todo fomentando prácticas saludables en relación a la alimentación y la práctica de ejercicio físico

en el año dos mil doce hay que destacar la estrategia de promoción de la salud y prevención en el marco del abordaje de la cronicidad en el sistema nacional de salud la creación y puesta en marcha del observatorio de la nutrición y estudios de la obesidad

y este año como ya anunció la ministra en una interpelación reciente

la oms insiste en la necesidad de implicar al conjunto de las administraciones públicas en la concienciación y en la prevención en ese sentido el plan de salud en el ámbito ya del país vasco dos mil trece dos mil veinte en el objetivo dos mil ocho hacía referencia a la obesidad

hablaba de desarrollar intervenciones para el diagnóstico tratamiento y seguimiento individualizado de las personas obesas

específico se hablaba sobre la obesidad infantil y juvenil y ya entre las acciones

la oportunidad de elaborar un plan de prevención de medidas basadas en la actividad física y alimentación saludable recientemente en el programa de gobierno suscrito entre el partido socialista y el partido nacionalista vasco partidos que componen el gobierno en la comunidad autónoma del país vasco entre las iniciativas se habla

con el objetivo de concienciar a la sociedad y establecer pautas de actuación

nosotros al hilo de los planteamientos también que se hacen desde la oms consideramos necesario

con medidas concretas en la mayor brevedad posible y en ese sentido le preguntamos al consejero

antes de que finalice el presente año besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zuri

el concepto de salud en todas las políticas y es que la única vía para la gestión de la salud en la población en general y del problema del sobrepeso y la obesidad en particular

euskadi dispone de un sistema sanitario de calidad solidario equitativo y eficaz pero para eliminar las desigualdades en salud es necesario reducir las causas que subyacen a un número importante de factores de riesgo los profesionales sanitarios especialmente la atención primaria trabajan desde hace años sobre estos factores de riesgo para intervenir sobre lo que se ha venido en llamar

de las causas para el departamento de salud es especialmente importante la promoción y la prevención de la salud por ello insistimos y tenemos iniciativas para fomentar estilos de vida y hábitos saludables en relación con el tabaco el alcohol el ejercicio físico o la alimentación entre otros supongo que en la actualidad a nadie le extraña oír que la obesidad se ha convertido en un problema de salud pública

importante del mundo la obesidad es la consecuencia más visible e inmediata de una mala alimentación y la falta de actividad física y se prevé

que en el dos mil veinticinco una quinta parte de la población mundial sea obesa lo que ha llevado a organismos internacionales y gobiernos a proponer estrategias y tomar medidas

además es indiscutible la relación entre alimentación y el estado de salud actualmente un porcentaje alto de las enfermedades crónicas están relacionadas o pueden agravarse

la presencia de determinados tóxicos y componentes en los alimentos ciertas deficiencias nutricionales o la ausencia de ejercicio físico en consecuencia resulta imprescindible realizar esfuerzos coordinados en todos los ámbitos de la sociedad para lograr modificaciones en los hábitos de vida y un cambio de tendencia respecto a la obesidad el departamento de salud del gobierno vasco consciente incluyó

del plan de salud dos mil trece dos mil veinte un objetivo concreto y leo textualmente el diseño e implantación de una estrategia de alimentación saludable que tenga presente las desigualdades sociales y especialmente las de género pronto estaremos en condiciones de presentar con mayor nivel de detalle el proyecto

se trata de un programa que estamos elaborando de forma coordinada con otras instituciones colectiva y creativa también un programa que pondremos en marcha para dar respuesta

asociadas a la alimentación de las personas para alcanzar dichos objetivos el plan contará con cinco líneas de actuación que a su vez desarrollarán diversos proyectos porque el plan de salud además de incluir entre sus objetivos el diseño e implantación de una estrategia de alimentación saludable

un objetivo específico y voy a leer textualmente también reducir la obesidad infantil y juvenil mediante un plan de prevención con medidas basadas en actividad física

como he dicho previamente estas políticas deben abordarse de manera transversal en coordinación con otros departamentos instituciones y también con la sociedad civil así desde nuestro ámbito competencial más directo el abordaje de la obesidad infantil especialmente desde la atención primaria

del contrato programa con indicadores concretos relativos a la medición de talla peso cálculo del índice de masa corporal etcétera también

para la reducción de azúcares grasas saturadas y sal en los alimentos previamente preparados asimismo estamos promoviendo

escolar y comunitario por tanto

le agradezco que traiga este tema al debate parlamentario yo creo que es importante y trasciende al propio departamento de salud le agradezco también la interpelación

adquirido para la elaboración tanto de las iniciativas para una estrategia de alimentación saludable como de un plan de prevención de la obesidad infantil

le invito también a estimular al ministerio de sanidad servicios sociales e igualdad para que además de campañas de sensibilización

en el resto de iniciativas en el conjunto del estado edozein kasutan lehen esan dudan bezala guk

eta obesitatea prebenitzeko jardunbideak ezarriko dituen plana hain zuzen ere un plan de prevención de la obesidad infantil cuyos objetivos principales serán

tanto para los profesionales sanitarios como para pacientes familiares y agentes comunitarios eskerrik asko eskerrik asko sailburu jauna

gracias señor consejero por la respuesta también por el tono y bueno le estimularé

a usted en relación con los compromisos adquiridos no solo en el plan de salud

que fue un hito en esta cámara porque fue un plan aprobado por unanimidad en esta cámara sí que es cierto con múltiples aportaciones por lo menos

grupo o un plan que tiene una vigencia de siete años dos mil trece dos mil veinte por lo tanto como decía esta interpelación está motivada

por estimular a este gobierno y al propio consejero al cumplimiento del plan de salud de las previsiones del plan de salud

por las propias previsiones y compromisos adquiridos en el programa de gobierno estoy de acuerdo señor consejero salud en todas las políticas por eso

el ámbito sanitario y que es necesario impulsar políticas integrales y que abarquen distintos

promover todo lo que tiene que ver con la promoción y prevención de la salud además soy una convencida de ello y sobre todo en que estas políticas tienen un importante impacto

de prevenir enfermedades futuras de costes también al sistema sanitario de impactos en la calidad de vida de los propios

que tenga que ver con el ejercicio físico con hábitos de vida saludables me parece

el compromiso de traer aquí la estrategia de alimentación saludable también contemplada en el propio plan de salud y en el propio programa de gobierno pero sí que es cierto que esta interpelación pretendía el abordaje de un objetivo más específico que es lo que tiene que ver

tiene impacto cuestiones que tienen que ver con la alimentación pero también tiene un impacto específico todo lo que

sedentarismo de los niños de las personas en edades tempranas tiene que ver

y del sedentarismo por lo tanto pues me alegra señor consejero que por una parte haya adquirido el compromiso de traernos esta estrategia de alimentación saludable pero también espero que usted adquiera un compromiso en relación

para abordar el problema de la obesidad infantil que como dicen los datos aunque vamos por el buen camino todavía queda mucho por hacer el impacto está ahí

esperemos que esto también sea una realidad en euskadi este plan

el abordaje de prevención de la obesidad infantil besterik gabe

como venimos debatiendo en euskadi como en todas las sociedades desarrolladas de nuestro entorno el porcentaje de niños y adolescentes con sobrepeso

y aunque estamos relativamente mejor que otros no deja de ser un problema importante

de la obesidad dos mil quince muestra en euskadi que los índices de obesidad de los niños y niñas están considerablemente por debajo de la media estatal

en concreto la prevalencia de sobrepeso y obesidad es del treinta y cuatro por ciento en euskadi uno de cada tres por lo tanto es un problema importante y la media estatal está en el cuarenta y uno por ciento

vemos que la obesidad infantil en euskadi está en el once por ciento mientras que la media estatal está en el dieciocho por ciento

uno de cada diez niños o niñas es un tema como para hacerle el caso que merece y desde luego no nos vamos a conformar con que nuestra situación

el mundo anglosajón por ello uno de los compromisos adquiridos para esta legislatura en el programa de gobierno pactado con el partido socialista de euskadi ha consistido en que desarrollaremos un plan específico de prevención de la obesidad infantil pero sin embargo hemos considerado necesario elaborar y presentar primero la estrategia de alimentación saludable

y que yo espero presentar en unas pocas semanas en todo caso

sobre todo serán sacar el problema del departamento de salud y llevarlo a la sociedad en general y al resto de las instituciones y establecer una guía

a pacientes familiares y agentes comunitarios una de las iniciativas previstas

que vamos a llamar de trescientos sesenta grados en comedores escolares porque a nadie se le escapa que hoy en día son muchos los niños y niñas que comen cada día

escolar pretendemos influir en el consumo que tiene en estos lugares para mejorar los hábitos alimentarios en la población infantil entre otras razones

por la edad en la que se desarrollan los gustos y hábitos alimentarios que luego se mantienen en la edad adulta y porque también somos conscientes que los hábitos y gustos alimentarios de nuestros hijos e hijas influyen de manera notable en la alimentación y en la preparación

pero debemos tener claro que se trata de un tema complejo que es necesario abordarlo no solo desde el ámbito sanitario y lo volveré a insistir

al conjunto de los ámbitos especialmente al familiar al educativo

alimentaria todo ello con el objetivo de prevenir la obesidad infantil

egun on compañeros parlamentarios compañeras parlamentarias uno no se siente bien claro después del punto anterior debido a mi propio sobrepeso pero bueno hagamos un esfuerzo se escucha por los pasillos

va a montar un gimnasio en el parlamento para que las horas que metemos

y sentadas se eliminen poco a poco bueno traigo un problema sencillo

que escribimos en febrero las condiciones han cambiado pero no he retirado la pregunta porque algunos asuntos se mantienen

que defendemos todos y todas las que estamos aquí estas cosas escuchábamos estamos también colapsados

a la vez en la urgencia del hospital de santiago en veinticuatro años que llevo trabajando aquí decía un médico

en la reorganización de álava del complejo hospitalario tiene unas urgencias

otras urgencias veintiocho boxes y doscientos veinte ciudadanos y ciudadanas promedios de atención en txagorritxu

y aproximadamente ciento cuarenta pacientes promedio de atención en santiago

casi toda tipo a que a los enfermos crónicos y ancianos se les complica con insuficiencia respiratoria

picos de más de ciento setenta prensa catorce de febrero toda la prensa de álava gente sentada gente mayor qué pasa que el servicio de urgencias de santiago es referencia para todo álava de politraumatismos

y de personas mayores de más de sesenta años todas las camas de reanimación están ocupadas todo el tiempo es un espacio pequeño para ofrecer atención de calidad a los pacientes

todos los días de enero y febrero se aumentó la plantilla

más espacio más profesionales más cobertura horaria parece que lo estacional lo coyuntural

parece que el ajuste que teníamos de plantilla y de recursos se solucionó y se ha mantenido por qué porque las plantillas que se renovaban cada semana mantenido y las camas y las unidades de evolución en concreto que duplicaron la capacidad de santiago se han mantenido quiero decir que parece y esta es la primera pregunta que parece que lo coyuntural no es coyuntural sino que es estructural y gracias a que se ha duplicado la capacidad

algunos problemas que comentaremos en lo que me queda luego se han mantenido esta reflexión de lo que es coyuntural y es estructural me gustaría que nos diese su opinión

el director de asistencia sanitaria el coordinador del programa

y yo mismo y expusimos creo que con todo detalle las medidas adoptadas para hacer frente a la epidemia de la gripe del año pasado

le diré que gracias al plan de contingencias previsto a las medidas

en función del pico epidémico a la profesionalidad de los trabajadores de osakidetza se hizo frente a la epidemia gripal que afectó a euskadi este año

un buen aficionado al cine cuando ha salido aquí me ha parecido que estaba usted confundiendo

pero no no fue eso lo que ocurrió horrela uria jauna hartutako

plantearemos como todos los años un nuevo plan de contingencias para el año próximo y como usted ya ha nombrado

permite yo le he hecho una pregunta señor consejero si

como plantilla de refuerzo como parte de la estructura de las urgencias del hospital de santiago y los seis nuevos módulos que se están ampliando en la llamada unidad de evolución que se ha confirmado que es una plantilla que es estructural no coyuntural para la epidemia

no vale para otros sitios de nuestras unidades en donde realmente el ajuste de recursos el ajuste de plantillas hay un pedido

una atención adecuada ahora mismo tenemos picos en el hospital de santiago ojalá no haya un accidente porque todo politraumatismo toda persona mayor de setenta años de álava

va a las urgencias del hospital de santiago ojalá

grave de accidentes por ejemplo de tráfico porque todavía tenemos cuatro
horas de espera promedio en gente que está esperando tratarse gracias eskerrik

espero sinceramente que no se pase usted cuatro años dándole vueltas a la epidemia de gripe del año dos mil dieciséis y espero que no tengamos un accidente imprevisible que puede ocurrir en cualquier momento como usted conoce como cuando gestionaba la comarca barrualde

y espero sinceramente que lejos de la demagogia ponga usted un poco más de trabajo porque me está preguntando por un problema de diciembre del año pasado

pero le aseguro que no todo es los recortes que usted dice no todo es dinero es planificación y gestión desde hace mucho tiempo

en los servicios de urgencias en las urgencias de araba vamos a pasar

a doce boxes y las salas de traumatología de cuatro

finalicen estas semanas y como usted bien sabe lo hemos planificado nosotros además en la sede de txagorritxu el nuevo edificio de servicios generales cuando esté finalizado tendrá

y veinte consultas solo para urgencias todo ello con el objetivo de mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y la atención a los pacientes alaveses con independencia

y tenemos una ley de turismo que precisamente viene a dar instrumentos jurídicos para dar una respuesta a esta realidad para evitar la masificación del turismo para evitar la oferta ilegal

para dar a los ayuntamientos instrumentos para corregir los posibles efectos perniciosos de este tipo

la ley ya está está una ley que su artículo veintisiete define como actividad clandestina aquella que no ha hecho una declaración responsable de inicio de actividad

existe un artículo noventa y cuatro que define como infracción grave el desarrollar este tipo de actividad clandestina y está el artículo cien en su apartado b que dice que las sanciones graves puedes ser acreedoras de multas entre diez mil uno

tenemos los instrumentos también tenemos una disposición adicional séptima porque no todo es hablar de medidas coercitivas o de castigos

con los agentes del sector para evitar que exista esa oferta clandestina y no estamos hablando solo de castigar también estamos hablando de prevenir de incorporar de hacer cómplices a las personas que en el sentido positivo de la expresión de hacer cómplices en el sentido de dar a este

ya existe un camino y para evitar que sean clandestinos y que sean una competencia desleal por tanto tenemos unos instrumentos tenemos una ley

pero es que de momento ni siquiera hemos sido capaces de poner en marcha esta ley y tenemos que hacer frente a una oferta clandestina de pisos turísticos que curiosamente

y por tanto no existe ninguna dificultad técnica en detectar dónde se están ofertando esos pisos que no están regularizados es decir he dicho antes que he mirado las ofertas de barakaldo que es mi pueblo es decir si un turista japonés puede encontrar un piso

entiendo que el gobierno vasco tiene que tener también los recursos para detectar ese piso y por tanto a su propietario o gestor responsable primero conocedor de que existe una legalidad que tiene que cumplir y si efectivamente no se cumple esa legalidad pues hacerle responsable en los términos que la ley establece y por tanto lo que nosotros entendemos es que si bien el fenómeno afecta de forma diferente a cada una de las localidades de este país según la tipología que tengan en relación al ámbito turístico

turísticos entendidos como un problema está fundamentalmente en donosti y en otros sitios no es un problema sino que puede contribuir a lo que decía precisamente pues en barakaldo

distintos al turismo más convencional pero que también pueden tener cabida y por tanto efectivamente en unos sitios son muy bienvenidos este tipo de ofertas

de saturación y unos problemas que ya se están percibiendo más allá del ámbito político incluso por la propia por tanto consideramos que a estas alturas y por eso le decía inicialmente que ya llega tarde siendo esta una cuestión absolutamente prioritaria para el departamento que usted dirige teníamos que tener desde hace tiempo encima de la mesa un diagnóstico y si no tenemos todos los datos podíamos tener estimaciones que usted para eso tiene la formación adecuada y saber que efectivamente

si la proporción es tres a uno de entre lo registrado y lo que efectivamente se ofrece pues podemos calcular si los registrados son mil y pico viviendas como mínimo tres mil cuatro mil cinco mil es decir una estimación que puede ser prudente

y necesitamos también dedicar los recursos desde su departamento necesarios

que recoge los intereses de todas las partes también de las personas que hacen una oferta legal de este tipo de alojamientos

es imprescindible que su gobierno haga un censo de las viviendas

que informe a sus propietarios de la necesidad de regular esa situación y que en caso de que esa regularización no se produzca

porque queremos que se preste un servicio de alojamiento dentro de la legalidad que aporte recursos fiscales

del sector para que luego los ayuntamientos y de hecho a través de una medida de euskal herria bildu la ley hace una reserva expresa al derecho de los ayuntamientos a poder legislar desde el ámbito urbanístico si hay saturación o no hay saturación

firme o fidedigno de cuál es la realidad
ustedes tienen que intervenir porque ya como decía antes van tarde eskerrik asko casanova jauna jaurlaritzaren ordezkaria retortillo jauna zurea da hitza

la cuestión que trae a debate la interpelación del señor casanova es ciertamente una cuestión interesante

y en otros desde imputaciones que no solo me sorprenden sino que debo rechazar pregunta el señor casanova que a ver que tengo pensado hacer para aplicar correctamente la ley de turismo a lo que si no fuera porque puede ser interpretado como descortesía podría responder muy simplemente aplicarla y finalizar con el estrambote cervantino

pero no haré eso he oído ya algunas veces en este parlamento eso de ya sabía yo que no iba a convencerle o la verdad es que yo no he venido aquí a convencerle pero yo y no es osadía

la ley trece barra dos mil dieciséis de turismo y que una de las razones para elaborar dicha ley era la regulación del alquiler de viviendas y habitaciones entre particulares ofreciendo un marco legal

en la ley seis barra mil novecientos noventa y cuatro de ordenación del turismo ya se regulaban las viviendas turísticas que fueron suprimidas en dos mil ocho

dice así la parte expositiva de la ley dieciséis barra dos mil ocho la presencia de otras figuras de alojamiento complementarias al alojamiento hotelero como las viviendas turísticas vacacionales

se presentan como un producto escasamente alineado con el nuevo modelo de desarrollo turístico concebido para euskadi basado en la calidad en la sostenibilidad y en la puesta en valor de nuestros valores culturales rurales y paisajísticos ocho hace de eso como dice don hilarión los tiempos cambian que es una barbaridad ocho años después se aprueba una nueva ley de turismo con las viviendas de uso turístico como precipitador

las que nos ocupan las viviendas y las habitaciones en viviendas particulares para uso turístico ciertamente la regulación de estas figuras se va adaptando a una realidad cambiante muy cambiante diría yo como demuestra la sucesión de modificaciones anterior de otro lado siguiendo las directrices europeas

recoge el régimen de declaración responsable así la ley debe garantizar que cualquier persona pueda prestar servicios turísticos en euskadi

la entrada en la administración turística de dicha declaración tiene dos importantes consecuencias uno habilita a su titular para el inicio de la actividad turística dos se inscribe en el registro de empresas y actividades turísticas de euskadi tenemos por tanto que en la inclusión de las nuevas modalidades alojativas en la ley de dos mil dieciséis

una previsión a la que usted señor casanova se refirió en términos muy positivos llama la atención que la ley no dedicara espacios a otras cuestiones sustantivas de la regulación turística de las nuevas modalidades alojativas

sin tan siquiera articularla en términos generales así sucede con la fijación de la capacidad máxima y el número máximo de plazas o con el régimen de funcionamiento y los requisitos y condiciones

el registro suponía un avance en tanto que en lugar de pretender que algo no existe por el procedimiento de no nombrarlo ahora se le daba carta de naturaleza y se sometía a derecho positivo

insisto piedra angular de la ley en lo que toca a las viviendas de uso turístico a la hora de trasladar decía las previsiones del legislador a la realidad de los hechos ha surgido

la principal deriva del hecho de que en lugar de crear un sistema de ventanilla única la ley parece atribuir a la administración turística el control del cumplimiento de todos los requisitos establecidos concretamente respecto a las viviendas de uso turístico la ley exige expresamente que se cumplan los requisitos en materia de infraestructuras urbanismo construcción y edificación de seguridad lo relativos al medio ambiente sanidad y consumo higiene y salud laboral en cumplimiento de la normativa

así como toda la demás normativa que le resulte de aplicación una vez presentada la declaración responsable la administración turística ha de comprobar la existencia de inexactitud

así como la disponibilidad de la documentación preceptiva o el incumplimiento de los requisitos que resulten de aplicación pero a la hora de ejercer efectivamente esta función de control

con otras administraciones esencialmente con los ayuntamientos y ello es así porque la materia turística se presenta en concurrencia con otras competencias municipales

a la autonomía local en algún aspecto y quizá como una vía para disponer dicha participación aunque de forma no muy eficaz la ley entra a regular cuestiones formales exigiendo por ejemplo que las viviendas para uso turístico dispongan de licencia de primera ocupación

la disposición de dicho documento en efecto su eventual incumplimiento no siempre pone de manifiesto una carencia de orden sustantivo o material

la administración turística ha de contar necesariamente con el concurso y la colaboración de la administración local cuyo informe acerca del cumplimiento de los requisitos que afecten a sus propias competencias

por todo ello estamos trabajando tanto con el área de urbanismo como con el de turismo de los ayuntamientos en principio de las capitales y particularmente

para elaborar después junto con eudel un protocolo de actuación que permita la colaboración de los ayuntamientos en el ámbito de sus competencias para la validación del registro

entre otras razones porque este es un paso previo imprescindible para afrontar globalmente las situaciones de clandestinidad es decir la de aquellas viviendas de uso turístico que no cumplan con la obligación legal de registrarse en cualquier caso y refiriéndonos ahora a esta casuística menciona usted en su interpelación al menos en la que ha pasado por escrito la cifra del registro que se le ofreció desde el departamento el uno de marzo de este año mil tres viviendas registradas he de señalar que a día de hoy

es decir mes a mes se siguen produciendo registros y de hecho en los últimos tres meses el registro ha aumentado en más de un cincuenta por ciento en cuanto a las mil setecientos viviendas que se ofertan solo en donostia según indica también en su interpelación

plataformas principales que comercializan este tipo de alojamiento

le diré que a día de hoy hay registradas en donostia un total de ochocientos veintiséis viviendas

en este punto debo añadir una precaución que considero necesaria al abordar esta cuestión la ley no ha previsto

que facilitara la adecuación al nuevo régimen legal no creo que fuera razonable fijar el plazo de dos años de adaptación que la ley nueve barra dos mil dieciséis de fundaciones del país vasco otorga para la adaptación de estatutos a sus previsiones pero tampoco

en una actividad que desde dos mil ocho había permanecido en situación

sobre esa situación en eso estamos de acuerdo considero prioritario resolver la problemática del registro y colaborar con los ayuntamientos en el impulso de ordenanzas municipales que aborden

pero eso no significa que se ignore la actividad clandestina en este sentido desde el departamento venimos desarrollando

desde febrero hemos establecido contactos y reuniones y seguimos haciéndolo con diversos agentes implicados en esta cuestión tanto actores privados como plataformas comercializadoras airbnb sociedades de gestión o asociaciones hoteleras

con agentes institucionales básicamente ayuntamientos y haciendas forales en segundo lugar desarrollo normativo de la ley de turismo comprometiendo para este año la elaboración de los decretos que afectan

en tercer lugar diseño de una próxima campaña informativa sobre la obligatoriedad del registro de las viviendas de uso turístico y lo que comporta y en cuarto lugar sensibilización a nivel de los ayuntamientos sobre la necesidad de modificar o elaborar normativas municipales específicas para regular el impacto

coincidimos en la necesidad de gestionar bien el turismo en este caso

en ello estamos las cuestiones complejas usted mismo lo ha mencionado

exhaustiva y esta no lo era según sus propias palabras pero le aseguro que con la colaboración de los ayuntamientos y de las haciendas forales lo lograremos más pronto que tarde

como me respondió a las preguntas que le hice anteriormente y a la que hemos hecho referencia

literalmente las respuestas a todas las preguntas ahora por lo menos ha venido usted en persona

me sorprende el tono inicial de su respuesta

y no digo que esté haciéndolo a malas o con mala fe lo que le estoy demostrando

porque la ley obliga a que las viviendas que ofertan pisos de alquiler turístico o habitaciones de alquiler turístico

y usted ha dicho que luego el gobierno tiene que hacer una serie de comprobaciones efectivamente pero una vez que se

por tanto no se trata de que estas viviendas hayan tratado de registrarse y que por lo farragoso del procedimiento administrativo no hayan podido acceder

es que estas viviendas no han presentado la declaración responsable y por tanto no están cumpliendo la ley

yo le puedo dar el beneficio de la duda entender que no es una falta de voluntad pero de facto

no se están registrando todas las viviendas que están haciendo una oferta de alquiler turístico y por tanto la ley no se está cumpliendo

no decir aquí en castellano cervantino o en esperanto que está cumpliendo la ley y luego se queda tan pancho pues no no se está cumpliendo y si faltan recursos

pues bienvenidas sean las explicaciones que usted nos está dando y que han tenido que ser con motivo de esta interpelación ante un tema que crea no voy a decir alarma social generalizada pero por lo menos en el sector está generando muchísima preocupación

por los efectos indeseados de la masificación del turismo que ya estamos empezando a padecer y por tanto creo que era su responsabilidad no esperar a una interpelación parlamentaria

y acudir a esta cámara o si lo prefiere a un medio de comunicación y explicar lo que tiene que hacer o lo que quiere hacer

ahora vemos que tiene un plan que tiene un plan y ese plan cuando lo tengamos por escrito cuando

o si se nos va a presentar de forma más detallada quizá tengamos que pedir también su comparecencia en la comisión de turismo y comercio y en ese sentido ya podremos discutir

hay una ley que no se está aplicando y yo entiendo que por lo menos en una fase inicial de la aplicación de la ley es decir en el exhorto a las personas que están ofertando este servicio dentro de la clandestinidad hay que dar pasos y se pueden dar pasos independientemente de que luego haya que hacer

casi un año y la actividad se define la ley

ahí no hay periodo de transición la ley ha entrado en vigor y a partir de la entrada en vigor de la ley

y teniendo en cuenta que no se busca perjudicar a la persona oferente de buena fe de este servicio ni ir con la multa por delante no se busca eso lo que se busca es en un periodo prudencial de tiempo terminar con una oferta clandestina que supone un fraude a hacienda

pasando por ventanilla y que priva a los ayuntamientos de instrumentos de conocimiento de su propia realidad a partir de los cuales luego pueden regular este fenómeno de una manera u otra

por ciento del parque residencial está destinado a viviendas de alquiler turístico y el cinco por ciento

el cinco por ciento de las viviendas ya van destinadas al alquiler turístico porque el setenta y cinco por ciento de los pisos turísticos en donostia se concentran

en estas zonas y esto nos indica que en determinados aspectos de la política turística estamos llegando muy cerca al punto de saturación no en todo el país evidentemente y eso nos lleva

turística en esta comunidad que es la diversificación territorial y estacional pero en determinadas zonas ese fantasma

una ciudad muerta de éxito turístico pues está asomando ya

y para poder hacer frente a eso por ejemplo para que el ayuntamiento pueda aplicar la normativa urbanística el ayuntamiento de donostia

es imprescindible tener un conocimiento preciso de la realidad para eso es imprescindible que todo el mundo pase por ventanilla y ya hay una ley que prevé que hay que pasar cómo hay que pasar y qué pasa si no se pasa por

que haya hecho una presentación global de un plan más allá pero por favor

había afirmaciones que me parecían discutibles ha vuelto a deslizar alguna

o que estamos llegando a un punto de saturación me parece que no estamos ni de lejos en un punto de saturación turística como país no estamos en ese punto de saturación turística en el caso que menciona

efectivamente en algunos momentos sobre todo en algunos momentos del año no es la ciudad en sí sino en algunos momentos del año y algunas zonas de la ciudad pues efectivamente sufren

del turismo que conviene regular y que conviene gestionar correctamente para que efectivamente no nos muramos de éxito en esa tarea como le decía antes yo estoy absolutamente de acuerdo con usted estoy de acuerdo con usted también cuando dice que

para acabar con la actividad clandestina es necesario también contar un registro ese que dice usted

que efectivamente nos ofrezca seguridad jurídica a quienes se registran quienes presentan esa declaración

porque en la gestión de ese registro las instituciones locales no han sido tenidas en cuenta

por parte no solamente de instituciones locales sino también del sector el hecho en el registro podían aparecer viviendas que en función de las normativas municipales específicas a cada municipio en realidad no podían desarrollar esa actividad con lo cual se elaboraba un registro que necesitaba de una validación que además no correspondía solamente a la dirección sino que precisaba de la colaboración de los ayuntamientos porque entraba en sus competencias

tres meses después de haber aprobado la ley de instituciones locales que trata de garantizar precisamente la autonomía local en aquellos procesos desde gobierno o desde instituciones superiores

no sé si le entiendo o si no le quiero entender me parece que solamente me habla en relación a las viviendas clandestinas solamente me habla por decirlo así de

para que todos pasen por una declaración responsable que por cierto usted el año pasado decía que era una declaración sencilla este es un primer punto yo creo que es importante trasladar también pedagogía

verá el departamento ya ha hizo y ya aprobó esa labor de inspección de tratar de localizar

hacían o desarrollaban una actividad ilegal de viviendas de uso turístico lo hizo en concreto en dos mil catorce y lo hizo también en el dos mil dieciséis

primero la dificultad de localización porque no encontraba las viviendas como mucho calculaba la zona de la ciudad en la que estaba

cuando localizaba alguna llamaba y no encontraba al propietario de la vivienda

tiene que identificarse como tal no le daban información y en tercer lugar no encontró la colaboración

ni de los vecinos con lo cual el resultado fue cero ante esa situación reconociendo que efectivamente hay viviendas de uso turístico en situación de clandestinidad

calibrar validar el registro contar con la colaboración de las instituciones locales y de las haciendas forales creo que las haciendas forales son el primer elemento fundamental para controlar la clandestinidad y la elusión fiscal los ayuntamientos son el segundo elemento fundamental para gestionar

me consta que alguno ya está desarrollando ordenanzas específicas en la clave de limitar el número de viviendas de uso turístico y creo que esa es la buena dirección y en tercer lugar a la dirección de turismo lo que le corresponde o a este departamento lo que le corresponde es impulsar y lo estamos haciendo le digo desde febrero

como decía usted antes en un precio razonable a acabar con la oferta clandestina que efectivamente es una mala opción para el turismo y para
el uso residencial de nuestras ciudades muchas gracias eskerrik asko retortillo jauna

alicia koplowitz grupo omega capital erakusketa honen

factor económico cosa perfectamente comprensible por otra parte habida

el gobierno nada distinta de la desarrollada durante años por las instituciones vascas una política que se ha basado en lo fundamental

a partir de una concepción muy estrecha del fenómeno cultural

empresas que como es sabido cuentan con importantes desgravaciones

algún día habrá que regular en una ley de ámbito autonómico que al menos armonice las normas existentes por otra parte ya que usted no ha entrado al detalle

las deducciones fiscales que supone el mismo para petronor es decir qué tipo de deducciones y cuántos miles o cientos de miles de euros va a suponer de beneficio fiscal para esta empresa

creemos que es conveniente saber cuáles son exactamente las aportaciones netas que realizan las entidades privadas que participan es verdad que en eso ya ha dado una serie de datos en ámbitos públicos no vaya a ser que la colaboración

público para lo privado qué nos puede decir entonces

que recibe en lo relativo a imagen pública y propaganda deducciones fiscales u otras también nos interesaría que nos diera alguna información sobre

recientemente el alcalde de bilbao a declarado que tiene entre sus sueños y aspiraciones conseguir que la cultura sea una seña de identidad y motor de la economía de la villa con este objetivo en el punto de mira reconoció que entre los planes de futuro para la ciudad

también el sueño del gobierno vasco y el de su departamento es un sueño compartido por la ciudadanía o van a poner en marcha la máquina de propaganda para obligarnos a soñar resulta significativa esta manera de concebir la gestión cultural desde arriba sin participación ciudadana sin rendición de cuentas y al albur de los sueños de grandeza que suelen ser muchos

pero esta mercantilización de todo lo cultural como sabemos deja de lado muchas cosas las condiciones de los trabajadores de la cultura

que lo que es un derecho el acceso a la cultura se cumpla de manera efectiva

buenos días señoras y señores parlamentarios consejeras consejeros buenos días bien es recabar información ya lo tratamos de hacer

con motivo de la perpetración de robos en determinadas juntas administrativas pueblos de la cuadrilla de montaña alavesa el gobierno vasco afirmaba en la respuesta que tanto el modus operandi como otras características de estos hechos

la hipótesis de que se trata de la misma autoría un grupo organizado de gran movilidad que posteriormente también ha participado en robos similares

con los afectados que se han ido produciendo fundamentalmente esos robos en determinados

algunos otros pueblos y que han sido fundamentalmente sucedidos en instalaciones públicas

se han llevado algo de dinero han hecho destrozos también lo cual

espectaculares hayan tenido la incidencia de lo que es la economía de las juntas administrativas como puede ser

una incidencia importante y sobre todo cualitativa volvemos a ver que hay veces

lugar en zonas aisladas en núcleos rurales y esta situación pone de manifiesto la dificultad de custodiar a veces bienes públicos

de determinadas zonas de álava supongo que también hemos visto que hay planes especiales de la ertzaintza en relación con caseríos los baserris de gipuzkoa

en zonas especialmente aisladas y rurales y entonces en ese sentido

información sobre qué medidas va a tomar el departamento de seguridad para impedir que sigan ocurriendo robos en la montaña alavesa y en las zonas

la ertzaintza lo que va a seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora

investigar obtener pruebas detener y poner a disposición judicial a la persona presunta autora

que se han producido en montaña alavesa y en otras zonas rurales de euskadi pero desafortunadamente me temo que no es lo que más le interesa a usted

este tema parece que están más interesados en generar cierta alarma no

esa campanilla permanentemente para parecer que hay un montón de campanillas protestando por esta misma cuestión

el viernes pasado ya de cuál es la cuantía y la situación de estas sustracciones

de la cuadrilla de montaña alavesa dos intentos frustrados el caso está esclarecido ya

y va a seguir haciendo todo lo que tiene que hacer menos generar alarmas

percepciones distorsionadas de lo que es la realidad eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia

gracias presidenta gracias consejera yo alucino que usted prejuzgue cuál es mi intención o qué estamos generando si yo le he hecho una pregunta parlamentaria después de otra después de otra por escrito donde identifica cuál identificamos cuál es el problema y usted no lo describe desde luego ha habido alguna más porque payueta por ejemplo que en diciembre tuvo el

qué medidas efectivamente cuando pasa algo un acontecimiento de este tipo nosotros le tenemos que pedir al gobierno reacción cómo va a reaccionar qué medidas no diga qué pretendemos nosotros identificar los problemas y en este proceso hay un problema

son informaciones que recibimos a través de los medios de comunicación o esporádicamente pero usted la tiene que concretar

con normalidad qué medidas qué actuaciones para implementar en estas zonas aisladas en estas zonas son espacios públicos los que han sido atacados pues sin medidas de seguridad son edificios lógicamente más vulnerables sin vecinos en esas casas sin alarma sin mucho movimiento los días laborables bueno pues vamos a ver cómo actúa el gobierno vasco en relación a ertzaintza en relación con ese control

hay un contacto con otros cuerpos de seguridad del estado

o de las zonas limítrofes con burgos queremos saber si hay una información si se está actuando

hay alguna valoración qué grados de vulnerabilidad nosotros hemos vistos que en otra

un valoración de grados de vulnerabilidad háblenos de eso no nos califique
y no nos prejuzgue nuestras intenciones en relación con lo que es dar información a la población por favor eskerrik asko barrio jauna amaitu da denbora

efectivamente y usted lo ha dicho los datos hablan por sí mismos la evolución de

contra el patrimonio en montaña alavesa desde dos mil trece a dos mil dieciséis ha sido negativa es decir en dos mil trece en la cuadrilla de montaña alavesa hubo un total de cincuenta y uno denuncias por hurtos y robos

la práctica totalidad de ellos efectivamente en centros sociales bares almacenes en fin anexos a viviendas afortunadamente ni un solo caso de robo con violencia e intimidación sin restarle importancia a todo ello desde luego

estamos en ratios equiparables a otras zonas rurales de euskadi y desde luego no voy a ser yo quien tienda a confundir con temas de seguridad con otras cuestiones

les he explicado en alguna ocasión me consta tanto por comunicación directa con los propios agentes

vecinos y vecinas que esto está recogido con especial satisfacción tanto por unos como digo por quien el servicio como por quien lo percibe y además tengo que decirle que

comisaria tienen una relación fluida constante con los responsables municipales con los responsables de juntas administrativas con responsables o referentes del sector primario y del mundo rural la comunicación es constante

y acabo de decirle que ha sido detenida ya una de las personas el presunto cabecilla de ese grupo que ha estado sustrayendo que ha estado actuando no solamente en montaña alavesa sino también en otras zonas de

de rioja y para ello en esta investigación se ha trabajado conjuntamente con guardia civil y con policía foral navarra por eso

le insistía seguirá haciendo lo que tiene que hacer todo el trabajo de prevención necesario cuando ocurre un delito

y siempre insisto siempre que se pueda evitar que se cometan delitos pero en cualquier caso insisto valorando y

y valorando insisto perfectamente la envergadura de las situaciones la envergadura de los delitos en este caso de los robos cometidos tanto en montaña alavesa como puedan ocurrir en otras

presidenta señoras consejeras señora san josé

de robos hace un momento o sea malas noticias aunque bien controladas por la policía autónoma

porque independientemente de que nosotros trabajamos en relación con la economía social su desarrollo su fomento desde el ámbito de lo que es lo público ya este parlamento encargó al gobierno una comunicación de la que debatiremos en su momento está en marcha algunas iniciativas parlamentarias que tienen que ver unas proposiciones de ley con el fomento de la economía social también la propia ley de cooperativas cuando viene pues es otro forzamiento pues ahora todo ello

de las empresas de economía social y que está dando sus frutos en el país vasco en euskadi y en el conjunto de españa pues vemos que el gobierno de españa está ultimando

apoye la creación el mantenimiento crecimiento innovación de las entidades de economía social así como su internacionalización esto es una buena noticia y además hecho en el marco de la unión europea en el marco del horizonte dos mil veinte de la unión europea además esta elaboración o este anuncio

es bueno porque yo creo que marca sinergias que las comunidades autónomas

pues puede llevar a cabo y yo creo que es una buena noticia

nosotros en ese sentido y en el marco de lo que estamos hablando de ese fomento de desarrollo de la

laborales empresas de inserción las mutualidades las cofradías las empresas agroalimentarias pues sí que quisiéramos saber cómo participará el gobierno vasco en la elaboración

de economía social que vuelvo a decir que a nosotros nos parece una gran noticia una buena noticia y que como también el gobierno vasco también tiene que hacer sus deberes y trabajar en relación con las estrategias de economía social pues cómo vamos a coordinar todo eso muchas gracias

eskerrik asko presidente andrea eguerdi on guztioi en primer lugar quiero agradecerle señor barrio el interés e implicación que demuestra usted de manera constante con la economía social en el departamento de trabajo y justicia tenemos pruebas evidentes de ello creo que le estaré demostrando así como los responsables directos del departamento

e implicación por nuestra parte y la acción decidida de impulso de la economía social en nuestra comunidad autónoma antes de ir directamente a la cuestión planteada

mi posición la del departamento de trabajo justicia y la de todo el gobierno respecto a la economía social

euskadi es un referente internacional en materia de economía social las empresas de economía social son una alternativa general a las empresas de capital

de una rápida recuperación en lo que se refiere a empleos cuando se han visto afectados por sus efectos además son empresas socialmente responsables y cumplen un papel fundamental en el desarrollo local

la doble condición de trabajador y de empresario hace más fácil la visión de la empresa como una unidad social de generación de riqueza que satisface los intereses de las personas que participan en ellas

especiales de empleo y empresas de inserción en euskadi generan más del diez por ciento de los empleos en nuestra comunidad y estamos dispuestos a seguir impulsando la creación de más empresas de este tipo señor barrio me pregunta sobre cómo participará el gobierno vasco en la elaboración de la nueva estrategia española de economía social

de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas se han puesto en contacto y de esa

el ministerio de empleo y políticas sociales está elaborando un borrador de plan estratégico de economía social con un horizonte dos mil diecisiete dos mil veinte

pedir el asesoramiento de organismos cualificados en la materia como son el centro internacional de investigación e información sobre la economía pública social y cooperativa

confederación empresarial española de economía social posteriormente se hará llegar a todas las comunidades autónomas para que hagamos aportaciones y sugerencias y por mi parte

y la total predisposición a colaborar en los términos que nos ha anunciado o de cualquier otra manera que concertemos eskerrik asko san josé andrea

es la clave es el elemento fundamental lo que forma parte de ese momento

que lo he hecho extensivo conocemos efectivamente que esta estrategia va a tener

arquitectura del documento y de la propia estrategia efectivamente como usted ha dicho

complementando desde el punto de vista investigador y experto esa propia estrategia y luego serán las comunidades autónomas efectivamente dentro del marco de la economía aquí euskadi

mucho que decir siempre se está a la vanguardia siempre se está a la vanguardia no solamente

hay elementos de referencia dentro de la universidad del país vasco dentro de deusto o sea que en ese sentido va a ser bueno además porque previsiblemente como va estar aprobada esa estrategia supuestamente a finales de año

de la propia comunicación del gobierno y desde luego ese es el elemento fundamental ahora en ese caso la coordinación la necesidad de coordinación

la interna entre nuestras empresas en nuestra autoridad común el gobierno vasco y su dirección de economía social pero también las instituciones forales

en la promoción económica y el desarrollo de la economía y adiestra desde luego

en muchos ámbitos no solamente en la cooperativa sino mucho más con el gobierno central con las comunidades autónomas y sobre todo con europa que ha calificado la economía social de piedra angular de la unión europea muchas gracias

gracias de nuevo señor barrio quiero dejar constancia de nuestra disposición para colaborar y coordinarnos con todos los agentes que tienen algo que ver

y vamos a informar al ministerio de los trabajos que estamos elaborando como son la comunicación a este parlamento y nuestro plan de economía social hemos colaborado en la reflexión estratégica de cepes

a las empresas de economía social y vamos a participar en la mesa redonda organizada en el marco de la asamblea general de la confederación española de cooperativas de trabajo asociado eskerrik asko